y ya ha hecho su propia relación de necesidades sus áreas prioritarias y ya ha anunciado su intención de incluir en sus presupuestos una buena parte

y además lo tiene claro es un reto de país el suyo de españa y además lo ha acompañado de un golpe de efecto mediático diciendo que se van a

empleos en base a la utilización de estos fondos sobre todo

zein enpresa sartu daitekeen ikustea pero aquí aquí se ha empezado la casa por el tejado ante la expectativa de los fondos

es que hicieran una especie de carta acelerada de los reyes magos

estos días ha sido una verdadera chapuza y en muchos sentidos en muchos sentidos en primer lugar

de país un debate sobre nuestras necesidades y siguiendo lo que nos mandaba la unión europea empezar esto abordando un amplio diálogo político en segundo lugar por haber encargado una lista

con nocturnidad sin publicidad mostrando de paso una incapacidad manifiesta de manejar esto desde las instituciones públicas en tercer lugar por la evidenciación porque ha quedado en evidencia la concepción de transformación de país que hay detrás de estos proyectos que se han elaborado entre

y algunos agentes desconocidos del gobierno o de los gobiernos

la concepción de transición ecológica que tienen algunos en este país donde entran bien de carreteras bien de túneles bien de trenes de alta velocidad

para hacer una transformación estratégica especialmente en los ámbitos

no me quiero encasquillar de todos modos en los proyectos concretos ha sido una chapuza también

difíciles de entender en los proyectos presentados en todos los planteamientos que hemos podido ver tanto en europa como en el estado por ejemplo la rehabilitación de viviendas

aquí con el parque de viviendas más envejecido de toda europa como se ha dicho a menudo esto no es un proyecto viable o necesario esto no tracciona empleo

ni consultado con prácticamente nadie dejando fuera a prácticamente

a la universidad al resto de agentes políticos incluido al socio de gobierno a la diputación de gipuzkoa

y la mejor muestra de que esto ha sido así ha sido el toque de corneta general que hubo después de que hiciéramos aquí la interpelación y después de que salieran a la luz tras la petición de euskal herria bildu del listado de proyectos

las diputaciones de gipuzkoa y la de araba diciendo que ellos también tenían un montón de proyectos aunque también es verdad y hay que decirlo que nos consta que varios departamentos de las diputaciones

trabajando a destajo otra vez deprisa y corriendo para envolver proyectos presentables

reconociendo que había podido dar una sensación de desequilibrio territorial adegi diciendo que el dinero tenía que llegar también a la pequeña empresa

el gobierno anunciando que habrá una oficina técnica para recoger más proyectos algo que sorprende hoy porque la enmienda que han presentado los grupos que sostienen al gobierno pues después de tanto haber hablado de la oficina técnica no han dicho nada pero voy más allá

subrayar algo de lo que se ha hablado poco porque el listado original que se envió a madrid en agosto coloca en el liderazgo de varios de muchos proyectos a empresas concretas empresas con nombres y apellidos se ha hablado ya mucho de los proyectos de iberdrola o de petronor para los que se pide para los que se pide desde el gobierno vasco transferencias multimillónarias

todas las normas europeas de la competencia las normas de la transparencia o incluso la ley de contratos del sector público tendría verdaderas dificultades esta lista para considerarse

cómo que dinero de todos los europeos para una empresa privada en concreto a qué aspiramos

no será al revés el proceso no será que tenemos que presentar

en base a una planificación estratégica pública y después hacer las licitaciones para que haya empresas que opten a llevar adelante estos proyectos las que teníamos en mente

o es que estamos tan acostumbrados a utilizar lo público como alfombra roja para los planes y los proyectos privados de algunas empresas muy concretas y pensamos que ahora en este proceso con europa de por medio esto también va a colar y los ejemplos son evidentes se ha hablado mucho por ejemplo del proyecto de iberdrola en este país hemos decidido que el hidrógeno tiene que ser un vector energético fundamental a mí no me queda nada claro

el plan estratégico energético apenas una mención muy lateral

el proyecto estratégico pero no ya nuestro como país sino que pedimos trescientos treinta millónes de euros para que desde europa vayan a petronor para que pueda llevar adelante este proyecto

para dar un titular y así a golpe de titulares vamos salvando la papeleta no eso sí que es vivir

diseñar la metodología adecuada y oportuna para culminar la elaboración de un programa culminar esto esto que ese ha hecho hasta ahora

político para la gestión de estos fondos es decir y taquígrafos para que se pueda votar a todo esto en base a un principio de igualdad

gracias señorías buenos días

siempre estamos con lo mismo referente al tema que nos viene a tocar hoy

a españa a fondo perdido las preguntas que a cualquiera se le ocurrirían

y para qué para la primera pregunta ya se sabe que hasta primavera del dos mil veintiuno

pero realmente lo que dicen en europa es que seguramente hasta otoño octubre del dos mil veintiuno no llegue nada aquí así que la primera cuestión ya está contestada la respuesta

para los vascos la segunda pregunta el cómo es donde cualquier ciudadano

cualquier persona pensaría que tantísima cantidad de dinero se empleará para reparar los daños económicos que ha causado y que está causando la pandemia

pero resulta que no que esto de aquí en euskadi

unos pocos si seguimos con la gestión que están llevando a cabo ustedes y a decir los de siempre

muchísimas empresas muchísimas sociedades vascas que siempre están apoyadas y bendecidas por la mano de los gobiernos que ustedes

y no voy a citarlas porque quedaría feo pero todos sabemos de qué estamos hablando qué porcentaje yo hago esta pregunta qué porcentaje real de toda

va a recibir la sociedad vasca las familias vascas van a reconstruir el país de esta manera y es cierto que hay familias que de forma directa o indirecta están relacionadas con estas empresas citadas en el informe de

pero no llega a todas este es el programa que tienen ustedes de gobierno para reconstruir el país después de esta pandemia que nos está faltando a todos

no será ni justo ni equitativo ni va a llegar a las familias ni vamos a ser resilientes como piden

mire sabemos perfectamente qué es lo que no hay que hacer con un plan de recuperación económico a todos no suena el plan e de zapatero se utilizaron cantidades ingentes de dinero

que para nada impulsaron la economía del país ustedes quieren repetir un plan e euskadi los vascos nos merecemos esto pero lo importante es que estamos a tiempo hoy empieza el plazo el quince de octubre en pieza el plazo para presentar los borradores de los estados

para financiar los proyectos que crean oportunos y aquí me viene a la mente las palabras que tuvo el señor urkullu que no está aquí ahora mismo pero de la mano tendida

dónde han estado este proyecto que ustedes contrataron

para decidir cuáles eran los proyectos que se iban a presentar al gobierno se cerró el doce de agosto ustedes ya tenían ese informe estaba la mesa permanente ustedes podrían tranquilamente haberse puesto

queríamos qué se quería en el país vasco para euskadi qué plan íbamos a formar para euskadi cómo íbamos a recuperar euskadi ustedes no han tratado con nadie

y seguimos adelante y esto no puede seguir así nosotros

sigan así voy a ir incluso más allá y quiero

lo que voy a decir ahora y quiero que lo entienda muchísima gente pequeños empresarios que no saben hasta cuándo van a poder resistir esta crisis

sus comercios no saben si van a tener que cerrar su hostelería no

y un plan de estas características lo que tendría que hacer es apoyar a todas esas empresas todas esas directivas todas esas

empleo y se recupere con resiliencia la economía del país vasco y ustedes no lo han hecho pero ahora estamos a tiempo ahora tienen que dialogar tienen la obligación de dialogar porque si no qué gobierno están ustedes formando

pero vamos a ver y voy a centrar un poquito lo que yo estoy diciendo la unión europea pone a disposición de todos los estados miembros setecientos cincuenta mil millónes de euros

van a españa a fondo perdido y lo que viene a decir la unión europea es que quieren un instrumento para apoyar los esfuerzos de los estados miembros para recuperarse y reparar los daños y salir reforzados de esta crisis

sí señor las empresas en dificultades refuerza de los programas clave de la unión europea para extender las enseñanzas de la crisis y hacer que el mercado único sea fuerte y resiliente

lo más importante que hay que sacar de este asunto para centrarnos es que es una subvención que recibirá el gobierno de españa para los proyectos

y estamos a tiempo señores estamos a tiempo y lo importante

concurran a las subvenciones en la mejor de las situaciones

que encajen en la idea de generar un mercado único más fuerte y resiliente y que aceleren

sino que se tiene que dedicar a proyectos específicos la financiación y los proyectos europeos tendrían que ser empleados en mejorar nuestra competitividad la propia administración y modernizar las instituciones es decir es una financiación vinculadas hemos de aprovechar para modernizar el país y acometer las reformas siempre pendientes los proyectos específicos habría que elegirlos a partir de procedimientos abiertos concurrenciales es decir basados en los principios de transparencia y libre competencia por lo tanto señores déjense de opacidades y voy a nombrar a otra vez a la consultora price waterhouse cooper

en su filial española la cual parece ser arte y parte en el reparto de las subvenciones europeas para un proyecto

es un poco llamativo y entiéndame cuando lo que quiero decir es llamativo cada uno que piense lo que quiera por eso quiero hablarle con seriedad quiero hablarles a todos con seriedad y decirles que mi grupo nuevamente

y por eso proponemos que los proyectos que se han presentados al gobierno de pedro sánchez sean proyectos sobre todo consensuados con todos los agentes sociales para paliar remontar de verdad la crisis económica generada

miedo me da llegar tarde usted tuvo tiempo de tender la mano a los partidos y a la oposición tuvo tiempo de hablar con los agentes empresariales de euskadi

sin embargo sigue teniendo tiempo para

rehacer esos informes esos proyectos que vayan a madrid entiendo perfectamente la importancia que tiene

no les ha dado oportunidad de presentar sus proyectos ustedes ya de primeras lo que querían hacer era y

y ayudar a los que siempre quieren ayudar pero también hay mecanismos en de la ceoe

para que presenten sus proyectos y puedan acceder a las subvenciones esto es importante que todos los autónomos que todos los empresarios sepan que tienen una oportunidad en la ceoe que quizás aquí no se la hemos dado

ese proyecto no lo han hecho miedo me da que por no gestionar bien podemos perder o mejor dicho dejar escapar un porcentaje alto de la subvención de la unión europea

por eso nosotros proponemos la creación de un proceso abierto de concurrencia basado en los principios de transparencia y libre competencia para la asignación de los fondos next generation

desde el inicio de la pandemia los socialistas hicimos pública la necesidad de afrontar esta crisis como una oportunidad para salir de ella como una sociedad más cohesionada

las desigualdades la pandemia ha dejado en evidencia una profunda crisis a nivel sanitario económico y social a nivel mundial y por centrarnos más en el tema que hoy nos ocupa

sobre la base de un nuevo contrato social para la protección del estado de bienestar el cierre de las brechas sociales y un crecimiento inclusivo en todo el territorio dentro de los límites ambientales el plan de recuperación transformación y resiliencia presentado hace unos días por el gobierno de españa

una respuesta común a escala europea y a corto plazo con una política monetaria y fiscal que proporciona un marco de financiación adecuado para las respuestas nacionales protegiendo el buen funcionamiento del mercado común para que todas las empresas puedan operar en las mismas condiciones y desarrollando además protocolos comunes de seguridad y salud y también en lo que ahora mismo nos importa ha proporcionado a medio plazo poniendo en marcha un ambicioso fondo de recuperación y resiliencia a la altura de lo que precisa el proceso de reconstrucción de las economías en el mundo postcovid a partir del dos mil veintiuno desde euskadi se envió en mayo tanto a la comisión europea como

un documento denominado visión vasca para un plan de recuperación de la unión europea en el que se ponía de manifiesto la necesidad de esa respuesta europea mediante un plan de recuperación

a la fuerte contracción de la economía europea en su conjunto y que favoreciese la restitución del mercado interior y el pasado veintiuno de julio se alcanzó un hito histórico

europeo para movilizar como respuesta a esta situación excepcional setecientos cincuenta mil millónes de euros financiados mediante la emisión de deuda comunitaria

billones del marco financiero plurianual dos mil veintiuno dos mil veintisiete va a permitir abordar un volumen de inversiones sin precedentes en los próximos años el nuevo fondo de recuperación next generation europa permitirá a españa movilizar un volumen de inversión con una previsión de hasta

y créditos en los próximos seis años lo que supone un once por ciento

ante la comisión europea teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas a cada país así como el potencial de crecimiento la creación de empleo la resistencia económica y social

como un proyecto de país que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo para reconstruir

a los retos de la próxima década y el gobierno vasco y así lo expresa el acuerdo de gobierno de uno de septiembre el objetivo clave en la actual coyuntura es la implementación y refuerzo

así como la reconstrucción social y económica de euskadi que permita preparar a la sociedad vasca para todos los desafíos emergentes que la pandemia no ha hecho más que acelerar

con los objetivos del gobierno de españa en la modernización de las economías en la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo para la reconstrucción económica sólida

y para responder también a los retos que tenemos ante la próxima década y con ese afán se está trabajando en la elaboración del programa de recuperación y resiliencia de euskadi el llamado

e interinstitucionales así como de los proyectos público privados que puedan encajar en ese marco que ha establecido la unión europea

son primero definir el planteamiento estratégico y marco conceptual a cargo del departamento de economía y hacienda para recoger de forma vertebrada de forma coherente y cohesionada las actuaciones que se programen hasta dos mil veintitrés y que se ejecutarán hasta dos mil veintiséis

con los criterios establecidos por la unión europea en su apuesta por recuperar en términos de temáticas contenidos plazos hitos e indicadores de seguimiento

deben ser proyectos que respondan a nuestras necesidades presentes y futuras

de los proyectos a incorporar en ese programa que corresponde al consejo de gobierno

todos los departamentos inversores y además el departamento de economía y hacienda y la propia lehendakaritza

objetivos generales van a tener en cuenta diez temas o palancas el aumento de las energías renovables el apoyo a la movilidad eléctrica la rehabilitación y eficiencia energética

la mejora de servicios en la nube el big data el aumento de las competencias digitales el refuerzo de la ciencia del sistema sanitario

de forma que estas palancas y ámbitos temáticos se alineen con los siete ámbitos emblemáticos que ha planteado la unión europea con relación a la gestión del fondo next generation partimos del hecho de la adscripción

de la política de cohesión europea planificación y análisis de fondos europeos de recuperación y resiliencia

capaz de dar respuesta al ingente reto multinivel y que tenga en cuenta

a nivel estatal se han determinado fórmulas relacionales de la administración del estado con las comunidades autónomas y con las entidades locales reactivándose diversos elementos de gobernanza y cogobernanza como la conferencia sectorial de fondos europeos

varios foros o consejos consultivos como espacios de debate de asesoramiento y de seguimiento de los programas

la correcta ejecución y canalización de los fondos reforzar y crear estructuras de ejecución seguimiento y coordinación que permitan la colaboración interministerial público privada con las comunidades autónomas y con las propias entidades locales es verdad que aún

por eso y en las actuales circunstancias y nivel de desarrollo de los proyectos los socialistas vascos junto con los nacionalistas vascos hemos planteado una enmienda instando al gobierno vasco a primero

de un programa de recuperación y resiliencia de euskadi como contribución al plan de recuperación y resiliencia que el estado español deberá presentar a la unión europea en ese marco del mecanismo de recuperación y resiliencia que forma parte de la iniciativa next generation europa

deberá recoger de forma vertebrada coherente y de forma también cohesionada

hasta dos mil veintitrés y que se ejecuten hasta dos mil veintiséis

actuaciones que estén alineadas con los criterios establecidos por la unión europea en esa apuesta por la recuperación económica y la cohesión económica social y también territorial

del gobierno así como una organización capaz y flexible que dé respuesta al enorme desafío multinivel que va a suponer esa iniciativa del fondo next generation establecer también un modelo de interlocución

otero establecer un modelo de interlocución y en su caso integración de propuestas con el resto de administraciones públicas de euskadi agentes sociales y actores socioeconómicos con el fin de garantizar la coherencia la viabilidad de las iniciativas propuestas y permitir una implementación exitosa de ese programa en la comunidad autónoma de euskadi todo ello dentro del modelo exigido por la unión europea de plazos

y en cuarto lugar pretendemos que se dé cuenta a este parlamento de las actuaciones y proyectos que integren el programa de recuperación y resiliencia de euskadi e informar periódicamente a la cámara de su ejecución

ante un reto complejo en un proceso además incipiente en el que hay detalles y asuntos que todavía conllevan dudas que hay que despejar y además conllevan incertidumbres que hay que resolver este mismo martes veíamos por ejemplo como en el inicio de la negociación entre el consejo y el parlamento europeo

dos mil veintiuno a dos mil veintisiete al respecto del estado de derecho no hubo ningún avance

sin ningún avance por eso es relevante el compromiso del gobierno vasco de afrontar este reto que es complejo con responsabilidad y también desde un espíritu colaborativo interinstitucional y colaborativo políticamente tal y como expresamos en nuestra enmienda que consideramos que recoge y resuelve muchas o algunas de las inquietudes que planteó euskal herria bildu en cuanto al diálogo político y a la creación de una estructura para la gestión

a mí por lo menos me provoca siempre la moción una especia de sensación

con algunos actores diferentes no todos per opor lo tanto con pocas en el debate pero bueno volvamos al tema de hoy y a las preocupaciones del señor otero que a veces no solamente entiendo sino que comparto no en todos los aspectos

descataba mikel otero la importancia de los fondos propuestos por la comisión europea en el mes de mayo y aprobados por el consejo el veintiuno de julio pasado en su interpelación decía

y de la recaudación los mecanismos que europa ha puesto en marcha pueden ser de extraordinaria importancia para hacer frente a nuestros retos inmediatos

millónes de euros en tres años una parte de transferencias que son subvenciones a fondo perdido por un importe de

los proyectos no pueden ser simples ocurrencias de un día para otro yo creo que

planes muy pensados y en fase prácticamente de preproducción

ni debemos presentar proyectos simplemente porque ahora haya dinero europeo

iban a ser desarrollados en un plazo más o menos próximo pero que ahora con las ayudas de bruselas van a acelerar su puesta en marcha

el problema el proceso de presentación evaluación y aprobación de los planes de inversión y los tiempos

quedan cantidad de detalles por aclarar en su interpelación el señor otero cuestionaba el listado de proyectos que el lehendakari entregó al presidente del gobierno el presidente sánchez

que fue un trabajo de recopilación de proyectos de carácter institucional por una parte y de iniciativa

que potencialmente podrían lograr ayudas como las contempladas en las iniciativas europeas el objetivo del gobierno vasco cuál era que desde el primer momento hubiera proyectos preparados desde euskadi y que las prioridades del gobierno vasco

sánchez y así se lo trasladó el lehendakari en la última conferencia

presentará proyectos de calidad y que podremos avanzar en los diferentes ámbitos que marcan la unión europea transición ecológica transición digital y cómo no cohesión social

para el reparto de fondos tanto a nivel europeo como estatal y también aquí la comunidad autónoma debe ser la calidad de los proyectos

si el gobierno vasco tenía intención de compartir con los grupos de la oposición criterios de selección de proyectos para los fondos europeos mire yo estoy convencido

pero en este momento ya ha preparado un procedimiento para compartirlo primero de forma interna y

instituciones públicas y agentes económicos y sociales imagino por lo tanto que el procedimiento también tendrá cierta evolución

porque todos los proyectos como es evidente tienen que ajustarse a los criterios de la unión europea que en este momento

en cuanto a condiciones exactas es posible que el próximo día veintiséis con la conferencia de presidentes y la posible presencia de la presidenta la comisión la señora

haya más avances en la definición y también es posible que como ya lo ha dicho la señora corcuera la próxima conferencia sectorial de fondos europeos

pero en las próximas semanas el gobierno vasco va a elaborar un documento técnico las próximas semanas

a los criterios de europa sino que también combinen exigencias comunitarias con

y generación de oportunidades de empleo lo repito en este momento estamos en una fase muy inicial eta presazkoa da

es esperar no mucho pero esperar un poco a que el panorama se aclare

junto con el grupo socialista hemos presentado una enmienda a la totalidad cuyos términos no voy a repetir pero bueno donde se pide al gobierno

la implementación exitosa del programa coherencia

a este parlamento de forma sistemática creemos que nuestra enmienda es mejor y mucho más realista que la propuesta inicialmente por el señor otero

ondo egingo dira yo creo que habrá interlocución con todos los agentes pertinentes

de pronto el mundo cambió y con él nuestras vidas y nuestras prioridades la covid diecinueve ha dejado al descubierto las fortalezas

de nuestros sistemas productivos y de bienestar social apelándonos a la revisión y a la reorientación de nuestras políticas públicas

estas no son palabras mías son palabras del señor ortúzar quién no estaría de acuerdo con ellas

y todas estamos de acuerdo a nosotros al oír esas palabras

en un lugar en común y que habíamos adoptado la perspectiva de trabajar por la vida

y por lo común pero por desgracia estas palabras a la vista del listado que nos hemos encontrado de posibles inversiones a optar para el fondo europeo estas palabras no son más que lugares comunes frases hechas probablemente

el pnv en infinidad de declaraciones públicas al final siempre acabamos en lo mismo que es la iniciativa público privada dicho así

es parte de ese lenguaje que tanto se nos ha inculcado especialmente a mi generación

que el señor egibar resumió muy acertadamente

conocen ustedes algún ejemplo de generación de riqueza desde lo público nos espetó sí lo público genera riqueza lo que no genera son dividendos

ese sea el fondo de la cuestión cuando estamos hablando de estas inversiones que el pnv ha decidido incorporar en su carta a los reyes magos

de la carta a los reyes magos tiene mucho que ver con lo de republicanizar la monarquía

de financiación directa sin contrapartida a una serie de corporaciones vascas la mitad de la inversión como ya se dijo hace quince días dirigida a petronor iberdrola y el tav

asiste a determinadas consultoras o empresas para tener la capacidad inversora de las administraciones en ellas cuál ha sido el proceso que ha determinado que price waterhouse defina o recopile como se ha dicho aquí esa serie de

porque en la enmienda a la totalidad presentada se dice que se va a desarrollar una metodología para abordar el trabajo en común por parte de las instituciones y también los diferentes colectivos

del proceso sin ningún tipo de metodología definida previamente y de hecho ese documento de recopilación no se había hecho público y por tanto aquí falla algo en el planteamiento de la enmienda a la totalidad porque da cuenta de que es una respuesta a algo que hace quince días se presentó aquí y que si no no se hubiese planteado esa nueva metodología de trabajo de cara a la cooperación

y desde la sociedad civil por otra parte a qué se debe tanta precipitación si no está claro cuál va a ser el sistema de participación y tenemos que esperar

a qué se debe tanta precipitación en el envío de este borrador de recopilación de inversiones entendemos por un lado la urgencia

pero aún nos encontramos como bien se ha dicho aquí en fase de borradores

abrir ese proceso de diálogo con la sociedad para recoger otras propuestas en lugar de tirar del catálogo de viejos proyectos porque en fin nos parece un poco cínico decir cómo se acaba de decir que no podíamos abordar proyectos nuevos y empezar a trabajarlos sino que teníamos que partir de algunos ya elaborados

que figuran en ese listado fueran los desarrollados o trabajados a lo largo de los últimos tiempos

de la economía tras la pandemia requiere una mayor planificación económica

tomar decisiones en un horizonte temporal mayor entre todas y todos y sobre todo de inercias institucionales de larga data que nos han traído

hasta aquí reconocemos en cualquier caso la complejidad de ejecutar grandes partidas presupuestarias con un diseño encorsetado y que hay que diseñar y ejecutar

temporal muy limitado no es fácil y por eso se deben crear los dispositivos públicos necesarios para capitalizar esta oportunidad y cambiar de rumbo ahora bien si el reto es mayúsculo debemos estar a la altura no vale refugiarse en esa parte del refranero tan reaccionario y apelar a eso de

es decir las inversiones recopiladas en el listado presentado al gobierno central

nuevas oportunidades a abrir fruto de la cooperación entre instituciones y sociedad civil la situación es dramática y efectivamente la pandemia ha azotado

mejor preparados si no hubiesemos acatado como alumnos aventajados el austericidio de la pasada década si ese fue un error que ahora

como que nos endeudaremos hasta donde haga falta hagamos también caso del pasado de lo vivido y no apliquemos otra

fallido el ladrillo y las grandes corporaciones son la solución no no lo son ese modelo es frágil e inestable y lo han demostrado en las últimas décadas

cuando nos ha golpeado un virus no podemos delegar la responsabilidad de la recuperación nuevamente multinacionales y al capital extranjero esta fórmula ya nos ha dejado una economía caótica

y creciente desigualdad especialmente para los y las jóvenes

no se está trazando un nuevo plan sino que se está aprovechando para compensar la caída del ingreso fiscal

y ahora a la vista de la falta de recaudación se tira el endeudamiento y también de estos fondos europeos pero no para hacer una reconversión real de la economía

en el pasado no voy a entrar en la en la retahíla de inversiones que a nuestro parecer en muchos casos vergonzantes y que desde luego no cumplen los propósitos y objetivos que se han dicho aquí que persiguen los fondos europeos en fin podríamos entrar en bastantes ejemplos de ellos por ejemplo y ya que al principio de mi intervención mencionaba lo público privado mil setecientos seis millónes para tres proyectos público privados de iberdrola

de baterías de ion litio que ya se ha mencionado trescientos treinta millónes de euros para el

falta básicamente el desarrollo de una nave espacial

son las que nos van a sacar o las que van a hacer que cumplamos los objetivos marcados

dos mil treinta es absolutamente incomprensible que se haya optado por esta recopilación como se decía de proyectos creemos asimismo que debe haber una gran apuesta por reforzar primero los sectores que más han demostrado que son esenciales para la vida

de recortes de los últimos años creemos que un programa de empleo

tienen que estar ligado también con inversiones en infraestructuras adecuadas en estos sectores que son por cierto en ese listado

la sanidad y la educación en en cualquier caso si nuestro grupo

y apoyaría cualquier iniciativa que fuese en esta línea no es tanto por las críticas que también al listado de inversiones propuesto por el gobierno vasco sino porque abre la ventana a la y a la cooperación a nivel institucional y también con la sociedad civil hablan permanentemente desde el gobierno y también desde el pnv de esa nueva gobernanza

en algo nuevo es lo más viejo del mundo como los proyectos que se planteaban en el listado

vosotros y vosotras y nosotros básicamente no participamos una vez más una decisión crucial para futuro de euskadi que se ha tomado en el despacho de cuatro personas

en fin además consideramos que forman parte de una élite extractiva que no va a abordar desde el interés general el listado de inversiones

como se me agota el tiempo simplemente reiterar nuestro apoyo a la enmienda perdón a la propuesta planteada por el grupo proponente

al gobierno vasco y en este caso también a los partidos que lo sustentan que

el abanico y permitan también a la sociedad civil a los sindicatos a los grupos políticos aquí representados que participen en esa posible elaboración y que no
se limiten a consultoras externas que no están sujetas a ningún proceso garantista desde lo público eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

cuando hice la interpelación a azpiazu le dije

yo creo que lo que ha pasado después me ha dado la razón y me da la sensación de que

completamente o sea hay una parte de su intervención que se refiere a lo que ha hecho el gobierno de españa nos ha vendido el plan del estado yo lo podría entender no es el marco creo pero yo lo podría entender pero hay otra parte en la que usted nos ha no al gobierno eso se puede entender también

claro lo que hace es dar por bueno dar por bueno el proceso que se ha seguido

que le dicen que diga que se ha seguido porque no es el que usted nos ha contado aquí usted nos ha hablado de primero definir después recoger después seleccionar pero esto no ha pasado aquí lo que ha pasado es que se le ha encargado a una consultora privada

habla con tres empresas y una diputación se mandan corriendo a madrid sin consultárselo a ustedes y sin decirles lo que estaba pasando

hasta tal punto que después de que esto saltara

tres días después este domingo idoia mendia todavía decía que no sabía cómo se había hecho que no creía que se hubiera hecho

algo que se encargó a principios de agosto el diez de octubre el diez de octubre

y la vicepresidenta del gobierno vasco no sabe cómo se ha hecho esto y después viene usted a contarnos al resto un proceso que dicen que han seguido

no sé no sé qué más nos puede decir eta aguirre jaunari berdintsua esango nizuke o

preparados no se puede andar como pollos sin cabeza y resulta

hoy hoy que se abre el plazo en europa un listado de proyectos de los que la mitad están en desarrollo conceptual desarrollo conceptual que es un equivalente al se me ha ocurrido entonces

supuesta seriedad con la que se está haciendo esto que yo no veo por ningún lado

dónde modelo cuándo quién cómo modelo porque un modelo de interlocución puede ser pasaos

o sea esto es lo que nos piden ustedes que aprobemos o sea que dejemos todo en sus manos en la confianza de que ustedes lo hacen bien después del recorrido el histórico que llevamos con este tema

muy bien cómo no edozein kasutan edozein kasutan zuek

ezin dugula ahaztu hori no nos podemos permitir el lujo de fallar y si quieren corresponsabilidad tienen que dejar

y no lo toca nadie porque es demasiado importante lo que está en juego

y me sorprende me sorprende que ustedes vengan a decirnos que el orden sería escoger abrir un diálogo qué diálogo

borrador el borrador que ustedes le han preparado que ustedes han encomendado preparar

señor otero vamos a ver la clave aquí es la transparencia la libre competencia

en el mes de junio o de julio se constituyeron comisiones parlamentarias claro pero ustedes aprovecharon que aquí estaba el parlamento disuelto para y no recurrieron a la diputación permanente podrían haber recurrido a la diputación permanente para hablar de

que teníamos para el país vasco les ha dado igual es que de verdad vuelvo a hacer alusión a yo me lo guiso yo me lo como

ustedes han hablado ahora mismo de los criterios que han tomado en cuenta para los proyectos

porque todavía no sabemos cuáles son y lo siguiente que quiero decirles es primero

cómo lo van a hacer vamos a seguir trabajando de esta forma esta no es forma de trabajar en un parlamento serio esta no es forma de trabajar en el país vasco somos serios seamos serios y démosle la importancia que tiene son unos fondos para la recuperación del país vasco para la recuperación de los estados de la unión europea para la recuperación de españa

al oscurantismo a la opacidad y no es momento estamos en el momento de recuperar el daño provocado por la pandemia el daño económico provocado por la pandemia

bien gracias presidenta se ha venido reclamando durante mucho tiempo la necesidad de una europa proactiva

padecido y aunque el proceso es muy incipiente aún algunos parecen no querer verlo

la respuesta de europa ha ofrecido herramientas diversas herramientas financieras y económicas en estos momentos que son además fundamentales para convertir

en realmente una oportunidad por tanto es un hito histórico y los socialistas vascos

esta actitud por parte de europa insistentemente y como les hacía contamos con diversos instrumentos

con su propio reglamento con sus propios objetivos por tanto

concretar en unos cuando resulta que son una variada gama de fondos para esa transformación económica que se requiere para salir de la pandemia en las mejores condiciones y para no una caída para resolver una caída económica que ha habido a nivel mundial sabemos que además contamos con ese marco financiero plurianual

y además con el marco de recuperación y resiliencia que es el núcleo

europa por tanto sabemos que el plan de recuperación y resiliencia

lo que pretende es acelerar cambios transformadores y hacer grandes estrategias para recuperar

por la crisis e impulsar una mayor competitividad de las empresas

no se financien gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y que tengan además un impacto duradero sobre la resiliencia

va a promover la recuperación ecológica digital y resiliente de la economía ayer decía la ministra de hacienda ante una pregunta de su compañero el señor matute

autónomas a través del fondo riad europa para los dos próximos años y más de dos mil millónes dos mil trescientos o dos mil cuatrocientos no recuerdo ahora exactamente la cifra se los quedaría el ministerio sanidad para precisamente hacer una compra centralizada de material sanitario para luego reasignar a las comunidades autónomas que lo requiriesen y decía la ministra que a partir de la definición de los proyectos de recuperación y resiliencia habrá que ver cómo y de qué manera se van a conveniar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos

si no queremos verlo no lo vemos pero que esto está en un proceso aún incipiente es que es sí o sí eso no quita para que no se avance eso no quita para que no se trabaje y para que no se pueda además mejorar en lo que es el proceso de trabajo hay un compromiso por establecer un modelo de interlocución de integración de propuestas con las administraciones públicas vascas con los agentes sociales de euskadi con los actores socioeconómicos que garanticen además esa coherencia

que tiene o que vienen dadas desde europa para poder acometer estos retos con esos fondos pero euskal herria bildu parte de la consigna

y sin embargo los socialistas vascos estamos hablando y proponemos marcos de interlocución marcos de colaboración que según vayan concretándose

habrá que ponerlo sobre la mesa pero ustedes no es que tiene que ser ya usted decía señor

hablaban de ese modelo de interlocución cuándo quién cómo oiga en la oficina estratégica cuándo quién cómo cuándo quién cómo

a los agentes socioeconómicos de euskadi hoy se les dice por parte de esa enmienda que estamos sustentando

que todavía queda tiempo y que todavía tenemos la posibilidad de hacer un modelo de interlocución

con todos para entre todos coger los mejores proyectos elegir los mejores proyectos los que realmente supongan esa transformación para euskadi pero ustedes no ustedes a lo suyo al no porque no me voy a poner yo a matizar ahora lo que quiere el gobierno no no faltaría más yo con mi alternativa me quedo

y euskal herria bildu pretende ir a lo suyo sí o sí decía el señor soto antes

que bueno que no se haya hecho ningún planteamiento de apertura

hubiesen presentado una enmienda para que los grupos que sustentamos al gobierno

intentar al menos negociar el cauce está abierto el cauce se va a aprobar hoy con esa enmienda que hemos propuesto por lo tanto

una reflexión estratégica sobre proyectos que la comunidad autónoma ponga en marcha y materializar

decían los clásicos la euskal herria que imaginamos para el año dos mil bueno

y que eso suponía una falta un problema además de ser otra muestra de nuestra falta

eh bildu se haya dado cuenta que el camino de euskadi a bruselas pasaba por madrid

el motivo por el cual se abrió la oficina de representación

la oficina pasó a colgar del departamento de presidencia justicia y desarrollo autonómico y la función era la de apoyar y asesorar a la administración vasca en general además de actuar como órgano de relación y coordinación general con las instituciones europeas

el recurso del año ochenta y ocho del gobierno central la sentencia del tribunal constitucional

poco habitual nos dio la razón hoy en día la delegación de euskadi en bruselas trabaja con total normalidad y además yo diría que de forma muy eficaz pero además cuando en mil novecientos noventa y tres

permitiendo a entes subestatales participar en los consejos

o bélgica con las regiones pedimos que euskadi también se pudiera sentar en los consejos de la unión después de once años de explicaciones

como otros logramos por fin que en el año dos mil cuatro pudiéramos participar en cuatro de las diez formaciones sectoriales del consejo que es insuficiente

más totalmente de acuerdo seguiremos promoviendo la participación de euskadi en el proyecto europeo y creo que además así lo recoge el programa de gobierno

si ustedes desde mil novecientos ochenta y seis hubieran exigido esa representación al igual que nosotros o de otra forma yo estoy convencido de que hoy euskadi al igual que flandes hubiera no solamente participado sino que hubiera presidido más de un

no estaba por la labor su mundo no estaba en esas prioridades

y no en otras se hubieran ahorrado muchos años de sufrimiento y de dolor a este país

este último ejercicio de memoria histórica es de agradecer pero yo pensaba que estábamos hablando de futuro

en cualquier caso agradecerlo porque contextualiza ciertas cosas pero insisto yo pensaba que hablábamos de futuro y la mitad de la intervención ha sido para hablar de lo que no se hizo hace treinta años se ha hablado en una intervención inicial de que se iba a contar con los agentes pertinentes

se tendrá en cuenta a los agentes pertinentes para el proceso de cooperación y de

quiere realizar o materializar mediante los fondos europeos es que no sé qué agentes pertinentes son esos salvo el que ya ha participado que es una consultora externa sin ningún tipo de proceso

luego por otro lado hito histórico también se ha dicho sí efectivamente es un hito histórico

la apertura a la capacidad de endeudamiento ojalá eso se hubiese aplicado también como hecho histórico

todo lo contrario a lo que suponen los fondos europeos y también la capacidad de endeudamiento actual también se ha dicho

puede llegar a un acuerdo con elkarrekin podemos ezker anitza en relación con lo que proponían los grupos

al gobierno vasco hombre es que creo que o no nos enteramos

es que el proceso de participación para tratar esta cuestión se dio hace ya meses cuando se mandó ese listado de inversiones y que seguramente que en ese proceso como ya se ha dicho ni siquiera el partido socialista tomó parte

precisamente cuando más se habla de construir grandes consensos de país de que todo el mundo arrime el hombro

enorme trascendencia entre cuatro paredes eso es básicamente lo que ha acontecido aquí y yo creo que es la razón por la que se ha traído

esta propuesta de moción que a su vez proviene de una interpelación si no aquí no estaríamos hablando de articular nuevos mecanismos y además utilizando digamos ese lenguaje que no llega a decir nada porque no concreta básicamente el texto de la propuesta de los partidos que sostienen al gobierno

se ha dicho anteriormente un poco lo que se le ha ocurrido a los partidos que sostienen el gobierno para salir

momento que vivieron hace ya quince días y bueno y los días posteriores en relación con asumir ese listado de inversiones que se ha dicho que es una recopilación que son proyectos de inversión que venían trabajándose antes que no se podían inventar nuevos pero son muy concretos y tienen un poso también muy determinado y que estoy convencido de que al partido socialista algunos de ellos no le hacen demasiada gracia cuando la pandemia ha probado que es necesario revisar

de relocalización ustedes hablan en ese listado de redoblar la apuesta por la internacionalización low cost y todas las cartas

a poner alfombra roja a las multinacionales cuando todo el mundo sabe que de lo que se trata es de calmar la movilidad ustedes siguen apostando y aún más queriendo dedicar recursos extraordinarios a infraestructuras obscenamente caras

esperemos que ahora que ha asumido el señor arriola la cartera se termine cuanto antes y absolutamente caducas que no solamente emiten toneladas de ce o dos a la atmósfera durante su construcción sino que contribuyen a perpetuar el coche como principal forma de movilidad y cuando se trata y con esto voy a terminar

y mediano tejido productivo y comercial ustedes pretenden destinar la mitad de estos recursos extraordinarios

diseñados para un cambio de ciento ochenta grados en determinadas materias

que no satisfechos con tener beneficios multimillónarios están también en escándalos de todo tipo consideramos que estas inversiones no afrontan los objetivos planteados por los fondos europeos

en su caso esperemos que sea negativa llegado el momento y que se replanteen ese proceso que dicen los

en las próximas semanas que tengamos oportunidad tanto los grupos políticos de esta cámara como la sociedad civil de plantear iniciativas diferentes diametralmente distintas

guztietan como decía también en la interpelación

en otros debates no ha habido una reflexión sobre

lo que ha pasado en la pandemia y sobre los medios que se están

mejor dicho sobre los no medios que se están poniendo e incrementando los que

creo que usted ha tenido ocasión de hablar con varios berritzegunes en este caso me dirijo al señor consejero que está aquí presente y le

pandemia honengatik el termómetro de la paciencia también

de los no acuerdos que ha habido en los últimos años por ejemplo usted hablaba

la mesa de la función pública para seguir hablando de ese tema pero es que lleva son muchísimos años los que

diagnostiko bat egin diagnostiko azkar bat egin zergatik esaten dut hori porque todas las situaciones que se han vivido en

del confinamiento durante un verano también atípico y también de este comienzo de curso

han afectado de una manera u otra al alumnado y también al profesorado y también a las propias familias por eso proponíamos y está dentro también de la transacción que hemos llegado

no va a ser el diagnóstico que nos va a dar posiblemente la foto completa de la situación del ámbito educativo

pero sí que creemos que es muy importante porque estamos hablando mucho insisto de medios nos estamos enfocando mucho en los medios que es muy importante pero tenemos que hablar y había reflexiones yo creo de expertos educativos que tenemos en euskadi en las últimas semanas muy interesantes en torno a esos

de que este curso intente paliar y resolver algunos de los problemas

el confinamiento y esta situación que nos afecta a todos de una manera u otra están teniendo porque había distintos cuando

la situación tras el confinamiento en los inicios del verano había datos que no me atrevo

en ese momento que no habíamos sido capaces de llegar a las personas que estaban en sus casas y que por distintas situaciones no se ha llegado a ellas por tanto creo que es especialmente necesario es cierto

en la parte de la negociación que hemos tenido para no llegar a ningún

con eh bildu creo que es uno de los puntos que es importante y que bueno

se va a debatir pero bueno si el debate y el acuerdo va a ser el mismo pues tampoco auguro nada bueno para ese punto

que haya diálogo y acuerdo con los agentes tuvimos un debate hace creo que fueron dos plenos sobre el tema de la ratio y sobre el tema de los medios no hemos puesto el punto de llegada

de la ratio y con el tema de los medios pero sí que lo que estamos diciendo es que haya un diálogo

que ha comenzado en cierta manera pero todavía no se ha culminado y vuelvo a decir estamos hablando del inicio de curso

y afortunadamente la situación epidemiológica en las aulas no es

grave no es mala es preocupante pero

pero estamos ya a mitad de octubre y seguimos hablando de esto y seguimos por ejemplo con el segundo punto de la moción ikasleen

problema de los centros educativos que son los que se tienen que encargar

oportunidad perdida creo para un acuerdo que era posible en materia educativa creo que es posible no estamos hablando vuelvo a decirlo no estamos hablando del modelo educativo de la ley de educación en la que seguramente

de mucho y la que seguramente no es nada sorprendente que vayamos

nuestras propuestas y espero que por la parte de los partidos que sustentan al gobierno también sean con voluntad de acuerdo estamos hablando de nuevo

pancartas sino sonrisas evidentemente lo vuelvo a decir no he visto más sonrisas que las movilizaciones

de la pública por tanto sonrisas sí pero también para que la gente sonría necesita tener las condiciones materiales resueltas y vuelvo

volvía a decir usted también el tema de la el señor bildarratz en esa entrevista decía

entonces jóvenes lo que decían es por una juventud alegre y combativa también que creo que no es algo incompatible eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

esas mil personas que se iban a contratar ahora son un número de referencia para el consejero según su entrevista en numerosos medios este sábado ahí sí

es una referencia pero cuando queremos hablar de ratios entonces no entonces hay que sacar las cifras del debate

no hubiera habido presión de la comunidad educativa no hubiéramos escuchado ni siquiera plantear un aumento de la plantilla si las direcciones de los centros no hubieran denunciado públicamente el abandono por parte de la administración y falta de seguridad no hubiéramos visto al consejero reunirse con las direcciones y si en esas reuniones si en esas reuniones

no hubieran alzado la voz para quejarse de su situación no hubiéramos visto al consejero visitar ciertos centros in situ con su equipo si no hubiera habido una huelga y movilizaciones

si durante décadas no hubiera habido pancartas y movilizaciones en este pueblo a saber qué sería a día de hoy de nuestro sistema educativo asko aipatzen da elkarrizketa akordioa adostasuna

la tercera vez en tres semanas que oímos hablar de educación

volvimos a oírlo la semana siguiente con una interpelación de podemos y hoy

reconocer que la insistencia y la constancia son elementos positivos

no tanto yo no sé si realmente sirve de mucho hablar exactamente de los mismos temas durante tres semanas seguidas porque es como dar vueltas a una noria no pero bueno estamos para eso en este parlamento

su pequeña cuota de representación política y creo que eso motiva más que otra cosa la presentación hoy de esta moción pues bueno es que hablemos de los temas de educación porque nos parece como dije hace dos semanas y repito ahora

son prioridades básicas de este gobierno y porque

que hay que adecuar a la grave situación que ha dejado la pandemia como reconocía el señor martínez los datos ahora nos dicen que la situación se está afrontando de forma bastante satisfactoria para lo que se podía esperar antes de empezar el curso

para conseguir las máximas garantías frente al virus de más de

de los cerca de novecientos centros de enseñanza se ha producido con normalidad al menos con la normalidad que nos permite

y se ha hecho siguiendo unos criterios generales que ya planteó el ministerio de educación en el mes de junio y que volvió a plantear en el mes de agosto y que básicamente

más allá de discusiones competenciales todas las comunidades autónomas de españa y no era precisamente ni nuestro caso ni el de ningún otro territorio una situación sencilla de abordar

otros cuarenta y uno mil en formación profesional y treinta mil de bachillerato

importante pero es verdad que hay que reconocer que se han producido muy pocos contagios en el ámbito escolar ha habido más positivos

por contagios en el seno familiar y ha habido aulas que cerrar en algunos casos es verdad era de esperar por otra parte porque el riesgo cero no existe y no dejará de existir al menos hasta que hayamos controlado con una vacuna el virus

y los escolares aislados también en su mayoría por ser contactos positivos del covid como decía antes del ámbito familiar incluso hay un dato importante no ha descendido el número de alumnos contagiados en los tramos de edad

y dieciséis años desde que ha empezado el curso escolar lo que viene a refrendar lo que decía antes que gran parte de los positivos que no eran muchos en esos tramos de edad provenían del ámbito familiar y probablemente las horas que pasan en el centro han ayudado

de la pandemia a pesar de todo se están tomando medidas para garantizar una educación de calidad en unas circunstancias difíciles y para minimizar los riesgos de contagio el gobierno ha mantenido y no ha desmentido esa posibilidad

hacía referencia el señor arretxe para reforzar la plantilla en centros con mayor número de alumnos por aula y todo en este proceso es un proceso dinámico por lo tanto

a medida que se vayan necesitando a pesar de que eso lo reconocemos todos somos la comunidad autónoma con menor

por aula en el apartado de medios materiales el departamento educación ya ha adquirido

para ponerlos a disposición de los centros educativos no hemos completado el cien por ciento de los necesarios probablemente la situación como decía antes se va modificando a medida que van surgiendo las necesidades y se irán implementando aquellos equipos que sean

para mandar un agradecimiento expreso a toda la comunidad educativa tanto al personal docente como al no docente

y su dedicación este esfuerzo sería baldío no teniendo en cuenta

con el virus no sabemos todavía durante cuánto tiempo el confinamiento en su día

excepcional en el proceso de desescalada esperemos que no tengamos que hacer ninguna marcha atrás se han ido recuperando transportes trabajo presencial bares piscinas ocio y las escuelas ha sido de lo último que se ha abierto

de actividades hay riesgo cero seguirá habiendo riesgo

de la mejor forma posible eso sí siempre que sigamos garantizando que las escuelas funcionen porque nos parece que la educación presencial es absolutamente

porque valores habilidades sociales y destrezas difícilmente se aprenden a través de un ordenador puntualmente es verdad que la presencia a veces

y habrá que buscar y creo que el departamento lo tiene en mente alternativas viables y en ese sentido el acuerdo de gobierno recoge

que prestará especial atención y apoyo específicos especialmente a los menores más vulnerables

del acuerdo de gobierno el programa recogía la elaboración de un plan de inversiones tecnológicas en centros educativos para la modernización tecnológica la digitalización de las aulas y las nuevas tecnologías en la educación para dotar especialmente al alumnado carente de recursos

como ya dije anteriormente y recordaba el señor martínez hay que poner en marcha el procedimiento de negociación por aprobar una ley vasca de educación que será

difícil porque hay que afrontar los retos de futuro nosotros pensamos que en esa ley tiene que quedar claro el papel esencial de la escuela pública vasca y su carácter laico y la igualdad de oportunidades para el aprendizaje en todas las enseñanzas y todo eso se hará

y con la comunidad educativa algo que ya ha empezado a hacer el consejero de educación

al futuro incluso uno de los puntos de nuestro acuerdo habla de apostar por un diálogo permanente con la comunidad educativa algo que ha empezado a hacer el consejero

de la elaboración de un diagnóstico pero un diagnóstico en sí mismo es una situación estática porque hace una fotografía de un momento concreto

en euskadi como en el resto del mundo en una situación de pandemia no es una foto fija es una situación dinámica y muy movible y un diagnóstico sirve exactamente solo para el momento en el que se hace

nos da las claves necesarias para ir adaptando en una evaluación continua las necesidades del mundo educativo a los recursos que tenga que ir aportando la administración me parece que es una propuesta interesante la que se hace en la enmienda que hemos presentado junto con el partido nacionalista vasco

en la intervención quiero decir que evidentemente apoyaremos la enmienda que hemos presentado conjuntamente muchas gracias eskerrik asko pastor jauna

de los grupos que sostenemos el gobierno pero

lo provocan ustedes que duplican los debates ustedes sabrán por qué por qué lo hacen cuál es el motivo

cuál es ese motivo y creemos que flaco favor le hace a nuestro sistema educativo vasco egoera honek ez du

horrekin jarraitzea el departamento de educación viene manteniendo un diálogo permanente con la comunidad educativa

que esto no viene de la mano de las presiones de ciertos agentes

para que los centros sean espacios seguros lo están siendo y el departamento de educación va a seguir trabajando junto con la comunidad educativa para que siga siendo así con o sin pancarta va a seguir siéndolo siempre

nahiaz el diálogo es permanente con la comunidad educativa se comparten preocupaciones y necesidades y se analizan en busca de la mejor solución para cada centro

epidemiológico actualizado de situación de los centros educativos los últimos datos actualizados sobre la incidencia de la covid diecinueve en centros escolares de euskadi

con actividad educativa presencial suspendida y que hay un total de ciento treinta aulas clausuradas en noventa y uno centros educativos estos datos son de ayer hace dos semanas eran más las aulas clausuradas en más centros

el número de aulas clausuradas representa el cero coma setenta y cuatro por ciento de ese total de aulas

el esfuerzo que se está realizando por parte del conjunto de la sociedad y más concretamente por parte del ámbito educativo está contribuyendo a la evolución que mantiene

explicando a la formación que ha presentado la moción a debate por qué mi voto va a ser en contra hay que reconocer que mucho de lo que plantean que incluso se corresponde con lo que habría que hacer y efectivamente desde educación no se ha hecho pero ese último punto ese empeño de podemos de dividir la sociedad

los que piensan como ellos y sirvan para sus fines confesables e inconfesables malos todos los demás cómo que las ayudas para la educación pública

acaso no educan a vascos y españoles como los colegios y universidades públicas acaso no están sufriendo igualmente los rigores de esta pandemia no sé tal vez ustedes en su fuero interno opinen que se lo merecen al menos hasta que sus hijos vayan a un colegio concertado y entonces todo cambiará donde digo que la verdad y la coherencia nunca han sido compañeros de viaje suyos en su particular y sectario recetario educación pública encarna todos los bienes de esta tierra lo mejor de lo mejor lo público como la quinta esencia del bienestar de la justicia y del progreso

en cambio la educación concertada y la educación privada es el infierno en la tierra su afán de control no tiene límites les da igual que en colegios concertados y privados

en los mismos valores que en la escuela pública les da igual que peligren miles de puestos de trabajo porque esta crisis también les ha hecho daño más aún porque gente como ustedes les niegan un apoyo que también necesitan

otra duda ustedes reclaman apoyo educativo especial en materias como digitalización

no les parece necesario también en otros como matemáticas lenguaje inglés al menos tan importantes para la correcta educación de niños y no tan niños por lo demás la consejería vasca de educación ha tenido una actuación de juzgado de guardia dejando tiradas a familias a alumnos a profesores a personal de limpieza comedores equipos de dirección de los colegios públicos concertados y privados a todos una inacción irresponsable salvo para defender su autogobierno esa medicina que en estos momentos todo lo complica todo lo corrompe hablan ustedes de una necesaria cogobernanza con este gobierno

porque que el inicio del curso escolar no haya sido una ola de contagios no se lo debemos a la consejería de educación sino al ejercicio de responsabilidad de alumnos madres profesores y directores y no solo repito de la escuela pública también de la concertada y de la privada en definitiva podrán contar con nosotros cuando apuesten de verdad en la colaboración entre todos los agentes sociales y digo todos en mayúscula todos los del ámbito educativo

a cualquier opción de las existentes y que se ha aprobado además que funcionan sin duda mejor que su consejería de referencia intentaron aquí imponer su particular laicismo

y ahora pretenden acabar con nuestro modelo educativo para imponer el suyo solo público igual que en china o en corea del norte gracias eskerrik asko martínez

gracias señora presidenta señorías me alegro de que volvamos a estar aquí hablando de educación

a quince de octubre y seguimos debatiendo sobre el comienzo del curso

es estirar de manera forzada una interpelación insustancial

que recoge un puñado de temas inconexos y ampliamente debatidos no me extraña que cuando ha empezado el punto

estamos dilapidando recursos y alejando a esta cámara de las muchas y verdaderas preocupaciones de los ciudadanos

pero hay un punto de la moción que me resulta especialmente llamativo y agresivo

el punto y también la falta de referencia que algunos grupos han hecho a él y es la propuesta de destinar el cien por ciento de los recursos extraordinarios del fondo covid diecinueve a la enseñanza pública en la transacción se ha intentado torpemente corregir esta cuestión poniendo

la red pública es decir no les damos todos sino que les damos la mayor parte es que efectivamente acaso el covid solo ha afectado a la enseñanza pública

todavía desconocemos y si les ha afectado a todos por igual por qué hay que ayudar solo a unas familias y a otras no esto no tiene un pase de los trescientos setenta y dos mil alumnos

un cincuenta coma nueve por ciento se ha matriculado en la red pública y un cuarenta y nueve coma uno por ciento en la red concertada prácticamente la mitad

pretenden ustedes dejar a más de ciento ochenta y dos mil alumnos sin la protección del fondo covid y por qué

con la escuela concertada qué tipo de trauma

no será que les molesta porque supone libertad de elección y no les gusta que los padres puedan elegir

entonces tendrá que aguantarse con lo que haya y no se podrá

es esto lo que estamos proponiendo que no haya alternativas para elegir

detrás de este tipo de propuestas hay un objetivo que no se dice nunca que es eliminar la escuela concertada

es eso no así todas las escuelas podrán estar dirigidas por la ideología dominante les suena

eso es lo que pasa en los países totalitarios algunos de los cuales son su modelo

modelos autoritarios obsoletos y fracasados que pretenden importar aquí

en las dos hay de todo pero en la variedad está la libertad lo hemos dicho muchas veces

la educación concertada también es pública y merece la pena defenderla porque merece la pena defender la libertad mire señor martínez

creemos en la educación de calidad y en el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos dividir a nuestra red de enseñanza en dos bandos y enfrentarles

no es esto lo que los ciudadanos esperan de sus representantes públicos nosotros queremos lo hemos dicho muchas veces

o el modelo pedagógico en el que van a ser educados sus hijos queremos una escuela diversa plural y de calidad y eso pasa necesariamente por una red de escuelas mixta dinámica viva diversa

por eso cada vez que se ataque la capacidad de los padres para elegir la educación de sus hijos

de elegir y debe quedar muy claro cada vez que se ataca a la educación concertada

y por tanto estamos imponiendo un modelo y ya pasó la época de las imposiciones y de los modelos de sociedad grises uniformes dirigidos y monocromáticos

bueno eskerrik asko le iba a decir señor pastor

después de las últimas intervenciones creo que no va a ser el momento pero si quiere que no estoy en el momento de perdida la esperanza o perdida la ilusión los problemas continúan

pero es que como no hay por lo menos a nosotros y a los sindicatos y a otros

pesado cabezón y reiterativo si hace falta si es lo que

los grupos sociales y los grupos sindicales y las familias de la pública

es verdad que luego es un poco trampa porque no tengo réplica pero que me ilustre a ver qué sospecha usted de mí

nos conocemos ya hace cuatro años y otra cosa no pero iniciativas en materia de educación unas pocas tanto en el pleno como en la comisión acuerdos algunos incluso

voluntad muy propositiva creo que he sido bastante

se hable de no sé qué sospecha que hay de que tenemos alguna especie de contubernio

medios para la escuela en este caso y yo sí que invitaría a seguir bueno

a la propuesta este es el documento que envié ayer al resto de los grupos enmendantes y se lo he entregado también al señor gil hace unos minutos donde iban

ya estaban y la modificación del punto número cinco que

pero que siguen unos criterios objetivos priorizando la red pública cosa que dice la ley en vigor

que es donde está reflejado ese espíritu que recoge el punto cinco de la transacción que hemos firmado con bildu

mixto decirle que evidentemente nosotros traemos las propuestas que creemos oportunas al parlamento y que no tratamos de imponer a nadie pero más grave que esa intervención que tampoco me ha sorprendido ha sido la del señor gil el señor gil representante del partido popular ciudadanos en este punto ha dicho

por lo menos es lo que yo he entendido creo que os queremos imponer la escuela pública bien nosotros tenemos un

que la escuela pública tiene ideología que si solo hubiera escuela pública en este país esa escuela pública tuviera ideología me parece especialmente grave y le animo a

en su intervención porque la escuela pública ni en euskadi ni en españa ni en ningún país democrático tiene más ideología que los valores democráticos vigentes en este momento por tanto creo que ese punto y yo no tenía ninguna intención de hacer de polemizar ni de embarrar esta intervención ya lo ha hecho usted y alguna otra

en esta parte por los grupos que apoyan al gobierno

nos explique en su intervención si usted considera que actualmente como ha dicho la escuela pública en euskadi tiene una ideología concreta eskerrik asko

lortu da y se ha logrado entre todos y todas se ha logrado por las direcciones de los centros por el profesorado alumnado

pero también gracias a la administración gracias al trabajo de los ayuntamientos y gracias al trabajo sobre todo

con creces con creces pero eso no significa que tengan que ser diez mil o que tengan que ser tres mil

se verá se está viendo en base a la necesidad no en base a un titular

vamos a verlo vamos a analizarlo vamos a dar respuesta con ese recurso pero no a golpe de titular no bailemos con las cifras veamos qué se necesita y después actuemos

el gobierno vasco ordezkapenei dagokienez ahalegin berezia

con la enmienda transaccional nos hablaba el señor sobre sospecha sospecha ya lo sabe s se lo hemos dicho más de una vez no solo yo

pues buscar confrontación duplicar los temas a debatir aquí

pero es que encima en este caso no tiene ningún sentido porque es falsa la situación de hoy en día en los centros educativos no está en esa tesitura

no ayuda no aporta no ayuda a construir y tampoco ayuda

a la que han llegado ustedes hoy elkarrekin podemos y euskal herria bildu elkarrekin podemos el señor martínez nos decía que el diagnóstico que sí que lo compartían en su iniciativa

bildu con su enmienda con una enmienda pero que a su vez ya tiene presentada una proposición no de ley que el plazo para presentar enmienda vencía hoy pidiendo ese diagnóstico entonces empezamos ya

no tiene sentido si lo vamos a debatir la semana que viene en la siguiente desvirtúa totalmente

esa imagen de querer aportar y de querer construir

cuando de verdad debatamos esa iniciativa que ha presentado bildu no tiene ningún sentido por tanto sospechas todas porque se está viendo

le ruego que no manipule mis palabras yo no he dicho que la escuela pública

con toda claridad lo que he dicho exactamente y

es que si hacemos que desaparezca la escuela concertada entonces corremos el riesgo de que las escuelas puedan estar dirigidas por la ideología dominante como pasa en algunos países que usted conoce y seguro que usted es capaz de encontrar la diferencia entre las dos cosas

pero quiero aclarar algunas cosas porque este debate es muy interesante y a lo mejor algún día deberíamos de profundizar en él pero

el foco de la iniciativa señor arrese

me ha parecido oír que nuestro sistema educativo funciona por las movilizaciones las huelgas y las protestas

necesita tranquilidad excelencia constancia y participación y no necesita más broncas y más conflictos creo que no es la forma de gestionar ni el sistema educativo ni un país señor bildarratz la educación

bien gestionada y lo uno no quita lo otro ahora usted tiene la oportunidad de hacerlo de forma distinta pero no estoy seguro de que esté dispuesto a rectificar la trayectoria anterior

y la próxima ley vasca de educación será la prueba del algodón señora arrizabalaga

a mí me sigue pareciendo muchísimo pero lo que sí que es cierto es que

es mérito de los alumnos profesores y centros a los que creo que desde aquí es el momento de aprovechar

y nuestro apoyo más explícito posible gracias eskerrik asko gil jauna eztabaida

señora presidenta lehendakari consejeros señorías buenos días

iniciativa el día dos tuvimos la interpelación al señor arriola en relación con el

y presentamos a raíz de esa interpelación una sencilla pero entendemos que necesaria moción por el momento actual que viven nuestros territorios históricos en relación con el transporte ferroviario de viajeros fundamentalmente como todos

y lo que quiere ser este grupo en este momento es correa de transmisión de vecinas y vecinos de instituciones locales por ejemplo las del corredor

dónde están las competencias eso no lo hemos negado en ningún momento dónde están las competencias y por eso lo concretamos pero también está claro dónde está

de actuar e influir desde eso sí desde la colaboración institucional y desde el planteamiento pues a veces incluso de cogobernanza en lo relativo a la pandemia porque la reducción ferroviaria tantos vecinos y vecinas del país vasco

a los que tenemos que aludir no esta situación la situación de reducción

ferroviario de viajeros supone un paso atrás

y por contra supone un paso más para el incentivo de la utilización del transporte privado en concreto del automóvil

desde luego incongruente con las políticas públicas de esta nueva sociedad y de la

hemos hablado en todos estos años y que tenemos que garantizar nuestra moción es muy sencilla

no se puede rebajar más de lo que está es decir nuestra moción

al departamento de planificación territorial vivienda y transporte del gobierno vasco que es donde está la competencia de transportes pero bueno las políticas de transportes en este caso no tanto en la competencia

pero sí las políticas de transporte a que exija

interinstitucional institucional a que siga al ministerio de transporte

recuperación de todos los servicios ferroviarios que se venían prestando en el país vasco hasta la declaración del estado de alarma por covid diecinueve a través del real decreto que todos ustedes

que esto esta exigencia o este llamamiento o esta moción pero nada menos no no podemos rebajar desde luego esta declaración en relación con lo que

representantes locales nosotros

recuerdo de nuevo mantuvimos el pasado día dos de octubre la interpelación con el señor arriola con el consejero de transportes en este caso y en ella pues algo se constató se constató que no se han recuperado

media distancia y que no se iban a recuperar todos de momento eso fue una constatación o sea no se han recuperado y no se iban a recuperar de momento

no lo tenía en su agenda o sea que estaba claro y está claro en relación con las necesidades de los ciudadanos y de la

del transporte estaba claro que es necesario convencer a renfe en este caso también exigirle a renfe que recupere ese transporte y que lo reponga eso es necesario porque en esa interpelación se constató que de momento pues no lo iba a hacer

en ese sentido pues vuelvo a decir esa función

parlamentario y de este grupo es de correa de transmisión de la inquietud de ciudadanos ciudadanas y de representantes

y que nos han mantenido y que nos han trasladado

distancia está afectando gravemente a personas usuarias de los servicios en varias localidades

localidades también muy importantes y muy relacionadas

con vitoria por ejemplo no porque son pues localidades como

miranda de ebro pues la puebla de arganzón es decir íntimamente relacionadas a muchos efectos

entorno más inmediato pues necesitan el transporte público necesitan

a la universidad a algunos colegios de los

a diversos trabajos a muchos trabajos desde todas esas localidades a actividades comerciales sin ningún género de dudas

incluso pues mucha gente pues y sobre todo pues gente mayor pues incluso para asistir a la asistencia sanitaria

sanitaria hospitalaria que es el día a día

que obligan a esa utilización del transporte público

se nos ha dicho y el otro día también el consejero pues nos informó de eso

demanda de viajeros no pues ya hoy por eso se ve necesario y ve mucha gente necesario tomar alternativas la demanda está ahí

ya hemos visto cómo se toman las alternativas porque no hay transporte ferroviario las alternativas son coger el coche particular fundamentalmente

organizarse en relación con el transporte particular el reforzamiento o sea no la normalidad sino el reforzamiento de servicios de autobuses competencias de otras administraciones incluso teniendo que tomar ese servicio y reforzarlo o incluso como ya se ha dicho y como lo han puesto de manifiesto alcaldes de localidades del entorno

de determinadas personas pudiendo utilizar y habiendo utilizado con normalidad siempre el servicio y el transporte ferroviario está claro que el análisis

en la demanda del transporte no está en la demanda

ferroviario está el análisis debe estar en la recuperación de las frecuencias y en su caso de la mejora o sea vamos a centrarnos en la recuperación por lo menos

a quien corresponda de esa recuperación brevemente para ir concluyendo no sé salvatierra agurain

de ver cómo históricamente entienden ellos que ha empeorado el transporte público en la llanada alavesa siendo

pues está la gente desmotivada en relación con esta situación o sea que

además hablando como hablamos siempre de la despoblación del ámbito rural de la potenciación

con esas políticas públicas que deben incrementarla que deben preservarla tan importantes que son esos núcleos de población

cuestión muy importante en relación con tantos estudiantes

de núcleos conectados con vitoria por ejemplo por

está claro que los ciudadanos de estas zonas afectadas vuelvo a decir álava fundamentalmente pero hay más

porque viven aquí en vitoria y pueden coger el tranvía o los autobuses de línea que desde luego

pues bueno está claro que esos ciudadanos que viven en las zonas rurales pagan los mismos impuestos que los demás y tienen derecho a un transporte al que tenían derecho antes de la pandemia ya que la pandemia tiene muchos más efectos negativos para esta sociedad

individual y se debe desde luego asegurar la movilidad de las personas

interesante la entrevista que el otro día concedía el

y tenía razón comparto absolutamente lo que

del futuro lo decía además en la portada era el titular que el periodista había escogido para destacar la entrevista del señor arriola y es verdad es el transporte del futuro y aquí está pasando al revés en el pasado estaba mejor el transporte

en relación con las necesidades de nuestros territorios históricos y además en un momento en el que

circunstancias se ha normalizado bastante también la actividad comercial

no se ha normalizado y se ha retrocedido y se ha empeorado

y de media distancia son muchas las cuestiones el otro día nos referimos a ellas también en relación con que urge recuperar esas frecuencias

lo que supone para algunas personas en relación con más gastos de viaje

cuando esas frecuencias alteran no solamente

con otros territorios y con otras comunidades autónomas y otras ciudades o sea que se hace complicado en algunos casos y para algunas personas

como se hacía antes en relación con frecuencias con trenes y transportes o sea que en ese sentido

y un abandono por eso reclamamos del gobierno vasco también he tenido la oportunidad de seguir algunas comparecencias también

el gobierno vasco en este caso y que las diputaciones en su caso también se puedan involucrar en esa exigencia para recuperar lo que

ese es el objeto la finalidad de nuestra moción

pues bueno yo veía que algunas superaban incluso alguna era otro debate que probablemente tengamos posteriormente y lo analizaremos y lo veremos en relación con la utilización de los corredores y la implicación

otro debate y desde luego no se podía rebajar en relación con lo que se proponía por parte de los grupos que apoyan al gobierno porque

prestándose en el ámbito de las competencias puedo estar de acuerdo pero esto era una exigencia para que se recuperen esas y eso recuperar y exigencia no venía por ningún sitio en la enmienda a la totalidad que presentaban los grupos que apoyan al gobierno yo creo que lo más claro nuestra enmienda que vuelvo a decir es muy concreta muy sencilla exige una actuación decidida que la veamos es decir no solamente que se haga que nos puede decir que se está haciendo o

de este territorio de estos territorios afectados por la reducción de transporte que la vean y que sepan que eso es así y que desde luego formando parte

en relación con los partidos que están en el gobierno que se saque ese compromiso definitivo de recuperación inmediata de todas las frecuencias y de todo el transporte ferroviario muchas gracias

mahaiburu andrea bueno el señor carmelo barrio ha sido creo yo prolífico en las explicaciones respecto a su moción que

vamos a respaldar y espero que lo que sí que bueno nos sorprende que no hayamos no sé si es

decisión política que no ha tenido en cuenta la propuesta de transacción que les habíamos hecho desde

que tampoco difiere creo que tanto de la de usted y creo que la mejora porque

en la parte de recuperar nosotros vamos un poco más allá es verdad y usted tenía razón y nosotros hemos bueno si es la palabra además yo no tengo ningún problema en hacerlo rectificado con parte de nuestra enmienda como va a haber un debate concreto sobre ese corredor de altsasu

fácil me sorprende por una parte en este momento la posición

del partido nacionalista vasco y también la del partido socialista de euskadi porque estar en el gobierno no quiere decir que no le podamos pedir al gobierno de

ninguna marcianada porque sí que el recorte que se hizo en el momento que se hizo

del acuerdo pero creo que ahora en esta y más todavía en esta nueva normalidad o en la realidad en la que nos ha tocado vivir el transporte público si antes ya tenía una importancia

todavía más y más si vamos a hablar del cambio climático y de los objetivos de desarrollo

de emisiones tanto que se están introduciendo en las leyes estatales autonómicas y también

las directivas europeas el ferrocarril usted

no agotar todo el todo el tiempo es fundamental en cualquier sitio y en araba más especialmente porque bueno pues hay una serie de localidades a las que le da un servicio esencial que no puede ser suplido

por otros medios y era una situación bastante crítica la que había

y creo que el punto básico que nos debería de unir a todos los grupos es al menos recuperar lo que había en araba ese corredor de

miranda que ahora mismo está totalmente

yo creo que es esencial para la política de cohesión territorial y

usted señor barrio también lo ha explicado para el día a día de los y

para llegar hasta gasteiz que para bien o para mal es el núcleo que concentra la mayor parte de la actividad económica social

etcétera del territorio por tanto pensamos que es muy urgente que se recupere ese servicio y poner las bases yo creo que es fundamental

muy cercano y creo que ahora mismo habría que recuperar y mejorar el servicio que da

siendo consciente que formo parte de un grupo parlamentario que forma parte

también lo está proponiendo en la negociación de los presupuestos generales en la elaboración de los presupuestos generales del estado no me parece que sea ninguna marcianada vuelvo a decirle creo que podríamos ponernos de acuerdo todos los grupos de esta cámara en esa petición en recuperar al menos lo que había hasta

que se decretase el estado de alarma pero no es un tema solo alavés usted en la interpelación sí que solo se ha referido al tema

hemos incluido los tres territorios de nuestra comunidad autónoma

necesita de una mejora urgente para rehabilitar vuelvo a decir por lo menos la situación que teníamos anteriormente a que se decretase el estado de alarma

de maquinistas bueno es una situación generalizada en renfe que evidentemente no es responsabilidad de los diez meses de gestión de este gobierno pero que es una situación que ha heredado de que tiene que ponerle del gobierno español me refiero y tiene que ponerle solución y además hay que renovar la flota

que da servicio especialmente en bizkaia y recuperar

que se han recortado y en este sentido me parece interesante que se traiga esta primera iniciativa sobre transporte va a haber otra y seguramente por nuestra parte también

presentemos alguna más y vamos a tener una comparecencia del señor arriola

en lo inmediato vayamos pensando también que si esa transferencia de ferrocarril va a llegar en esta legislatura

para al menos en esta parte de las cercanías poder llegar a un acuerdo de esos que se gusta llamar

en ferrocarril en euskadi de cercanías en los tres territorios históricos en este sentido álava

es sin duda el territorio que más abandonado ha estado en materia de ferrocarril en la parte de cercanías y creo inversión razonable seguramente

socialmente mucho tenga un servicio digno de llamarse de cercanías y que mejore también además tanto la vida de las personas como la vida en los núcleos rurales de araba

tenemos que pensar que ahora vamos a tener la competencia de ferrocarril qué vamos a hacer con todo eso por tanto yo creo que es un buen momento este inicio de legislatura para que bueno los grupos presentemos nuestras propuestas en ese sentido y bueno pues podamos llegar a acuerdos me sorprende la verdad el que no haya

en este punto y la verdad que no podemos respaldar la

del proponente por tanto tampoco tiene sentido votarla a favor

que eran y son necesarias para en este caso para los ciudadanos y ciudadanas que necesitan el tren para su vida diaria y creo que es un tema muy sencillo

interinstitucional y cogobernanza para remangarse y trabajar desde el primer minuto con las instituciones competentes para adecuar las frecuencias de los servicios ferroviarios a la nueva normalidad y lo ha hecho también en base a principios de intermodalidad trabajando

instituciones competentes en los diferentes territorios intentando y aplicando también soluciones a través de otros medios de transporte para los usuarios que han visto alteradas las frecuencias utilizaban habitualmente

también los principios de eficacia de eficiencia de inversión en función del uso de la demanda también deben estar presentes

interpelación el primer contacto se realizó con la diputación foral de álava como institución aglutinante de los intereses del territorio histórico y con competencias

y movilidad sin dilación esta cuestión también fue tratada por el propio consejero señor arriola

el señor josé luis ábalos en la reunión que mantuvo con él y con el secretario de estado en la materia pedro saura en la sede del ministerio

de la operadora ferroviaria sobre dicho asunto que cabe recordar una vez más que son los competentes en las líneas ferroviarias que ustedes mencionan

que como ya sabrán fruto de esas gestiones de esa colaboración de ese trabajo conjunto de ese diálogo de esa negociación entre instituciones renfe ya está recuperando algunos de los servicios regionales suspendidos en marzo como también le apuntó el señor consejero

obsoleta lo llamativo es que a pesar de que ya se lo anunciara el señor consejero hayan seguido insistiendo en la misma por si no tienen la información se han restablecido se van a restablecer ya las siguientes líneas el tren

a las siete veinte que llega a la estación de vitoria a las siete cuarenta y seis

arriola que venía siendo utilizado por unas trescientos cinco personas la gran mayoría el setenta y ocho por ciento procedentes de miranda en una de las más problemáticas precisamente por las dificultades para darle una alternativa

realizadas por este gobierno se hizo mucho hincapié en la necesidad de recuperar esa línea precisamente porque no había soluciones alternativas

el otro servicio que renfe va a recuperar es el del tren dieciséis doscientos cuatro que hace el trayecto inverso el de vitoria a miranda creo que de hecho ya

a miranda a las diecisiete a las catorce cincuenta y siete perdón que lo

personas en lo que respecta al corredor en madrid euskadi cubierto por los trenes de

del covid diecinueve ya están en marcha desde el pasado día nueve especialmente la frecuencia de los viernes que es más

vasca madrid vitoria san sebastián que sale a las diecisiete cuarenta de chamartín y los domingos el alvia bilbao madrid que sale a las diecisiete horas de la estación

por la ciudadanía vasca residente en madrid y viceversa de ciudadanos de madrid residentes en euskadi queda pendiente tal y como le dijo el señor consejero el tren

uno seiscientos irun vitoria gasteiz utilizado por las localidades de la llanada alavesa

de la ciudad fronteriza y que llegaba a la capital las siete cincuenta y ocho que hace función de cercanías también en gipuzkoa

oñati que no se ha recuperado la totalidad de las frecuencias afectadas durante la pandemia

absolutamente incontestable que se está trabajando para hacer posible la recuperación de la totalidad de las frecuencias que existían hasta el momento

que la demanda ha descendido de forma notoria fruto de la situación y que hay ciudadanos y ciudadanas que buscan otras alternativas o que incluso lo han dejado de utilizar por otro tipo de circunstancias pues es muy cierto y ahí están los datos de la demanda y de los usuarios en las líneas mencionadas en cualquier caso

circulaciones conforme vaya evolucionando la situación sanitaria y especialmente la demanda de los viajeros que lógicamente se ve afectada por esta situación tanto en los servicios regionales como en los de media distancia queda claro por tanto

a amoldarse la situación obligaba a adecuar esas frecuencias en función de del uso lo que antes suponía una normalidad

se adecúa como lo hacemos precisamente también las instituciones las administraciones para dar respuesta precisamente

y a esas situaciones pero también lo hacemos para gestionar los recursos con racionalidad recursos públicos que son de todos y todas y que están destinados precisamente a dar un servicio adecuado pero también medido y proporcional a la demanda y a las circunstancias en las que que trabajar en consecuencia mientras no se normalice la situación las distintas administraciones pues tendrán que trabajar coordinadamente tal y como décimos en nuestra enmienda a la totalidad principalmente para identificar con precisión el número de personas afectadas

algunas de ellas de transporte por otros medios con lo cual tendremos que buscar alternativas estudiar de qué manera se les puede dar un servicio que hasta antes de la pandemia se le daba con normalidad para que acudan como bien se ha apuntado en alguna otra

a su centro de trabajo a su centro de estudio o también a su centro sanitario y analizando la mejor la manera de dar respuesta a esta demanda aplicar los servicios desde criterios de proporcionalidad racionalidad y evidentemente dando un servicio adecuado a la demanda y a las necesidades

sino es una cuestión de gestionar desde la racionalidad pero sobre todo desde la colaboración desde el diálogo entre instituciones y desde la disposición a solucionar los problemas

trabajo conjunto yo creo que en ese sentido este gobierno tiene el compromiso de seguir haciendo ese trabajo a través del diálogo del trabajo conjunto con las instituciones competentes en este caso con las diputaciones forales con los ayuntamientos y también cómo no en el caso concreto que se apuntaba

de madrid sin duda alguna que hubiera habido posibilidad de transaccionar pues no lo sé nosotros lo desconocemos entre otras cosas porque nadie se ha puesto en contacto con nosotros para hacer ese esfuerzo de transaccionar y como comprenderán ustedes

de intentar una transacción si no hay voluntad por parte de los grupos enmendantes o en este caso del grupo

para terminar creo que el representante de elkarrekin podemos el señor martínez

actitud creo que nosotros hemos presentado una enmienda que se ajusta al espíritu que tiene este gobierno

y ofreciéndole el servicio más adecuado a la ciudadanía y lo que no entiendo es por qué ustedes estando tan perfectamente de acuerdo como ha dicho con la

la enmienda en su totalidad ni tan siquiera sin hacerle una enmienda en la que se añada algún tipo de cuestión que pudiera enriquecerla es decir ustedes la han enmendado de arriba abajo en cualquier caso mire a mí sí me gustaría que antes de calificar algunos actitudes como marcianadas

intervención repasara la enmienda transaccional a la que ha llegado con el partido popular

me contesta en la réplica y después le daré la respuesta correspondiente eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak grajales jauna

poco se puede añadir a estas alturas del debate no vamos a empezar a hablar de horarios

a las catorce cuarenta de hora alavesa hemos pasado de greenwich a vitoria gasteiz y además vamos a ser lo suficientemente generosos como para compartir ese horario con el resto de territorios

yo creo que ha quedado bastante claro que llevamos un rato hablando de algo que no es estrictamente una competencia del departamento que dirige el señor arriola y a mí en ningún caso señor barrio sabe que le tengo

en ningún caso dedicar a su moción los epítetos calificativos que su compañero

que estar dirigiéndonos al señor arriola para que exija al gobierno del estado algo pues me parece que ni en política ni en la vida

cuando estamos hablando de competencias que corresponden a diferentes instituciones en este caso en

e incluso los ayuntamientos implicados aquí lo que se necesita es aparte de un conocimiento suficiente

términos como cooperación conciliación cogobernanza diálogo acuerdo creo que son

bastante más importantes que las exigencias

comparto absolutamente o comparto en gran parte en gran medida el discurso que ha hecho usted lo mismo que comparto en gran medida el que ha hecho

ahora a partir de ahí pues obviamente como le digo no podemos o no queremos votar a favor de su moción porque no nos parece

lo mismo que a la diputada foral de transportes y movilidad es que trabajen junto al gobierno del estado en este caso que es el único responsable de que hayan desaparecido

para que vuelvan a ser lo que eran en el peor de los casos

sean capaces de hacer un análisis real de cuáles son las necesidades de movilidad que hay en este territorio como antes ya han hecho otras instituciones las nuestras el gobierno vasco la diputación foral de álava y nuestros ayuntamientos y se pongan manos a la obra incluso para mejorarlas

pero que nosotros nos pasemos media mañana aquí debatiendo sobre eso tiene un efecto limitado con esto no quiero decir insisto en que yo no le voy a decir a usted qué debates puede o no puede traer aquí estaría bueno pero la directa es

o acudir donde el señor ábalos directamente a través de nuestro grupo en el senado

saber por qué se han tomado determinadas decisiones y a partir de ahí como digo exigir

negociar llegar a acuerdos para que en el peor de los casos volvamos a la situación anterior y en el mejor podamos incluso

del uso de las infraestructuras ferroviarias en álava estamos ante la pescadilla que se

los horarios decaen y como los horarios decaen la gente no lo

es verdad y eso nos preocupa mucho igual que a usted tanto o más que a usted señor barrio no solo nos ocupa o sea no solo nos preocupa

la diputación foral de álava precisamente atendiendo a las zonas que se han visto más directamente damnificadas por estas decisiones se ha visto en la obligación en estos últimos meses de

la línea diecinueve de reforzar la línea trece de autobús precisamente para cumpliendo con no solo con sus competencias sino con sus incumbencias

para nosotros el transporte público es muy importante creemos que hay que fortalecerlo y para esto es muy importante

pero insisto yo creo que lo correcto es canalizarlo a través del congreso de los diputados o en su caso del senado

yo ya sé que soy consciente que aunque soy de un grupo que está en el gobierno le estoy instando a ese gobierno

usted siendo miembro de un partido miembro de un partido que está en ese gobierno lo que viene aquí es a decirle a otro que le exija a ese gobierno del que usted forma parte que haga algo eso es tirar la piedra y esconder la mano

haga lo que va a hacer el nuestro o lo que en su caso pudiesen hacer otros y dirigirse a ellos y lo mismo

bastante de acuerdo con la mayoría de las cosas que usted ha planteado aquí pero insisto

y es más no solo el foro creo que también el momento es el adecuado de los cuatro grupos enmendantes que hemos intervenido hasta ahora

tampoco hay que tener una bola de cristal van a votar afirmativamente a los presupuestos generales del estado otros dos grupos creo que hemos manifestado públicamente nuestra disposición para ello en el caso de su grupo es más yo le he oído últimamente varias veces a su portavoz decir que frente a la pared de hormigón creo que era la expresión hay dos gobiernos

aquí tienen esta oportunidad el otro es el de navarra perfecto porque

señor barrio tenemos un problema también con la línea de autobús

eskumena del gobierno de navarra pues creo que también

del transporte de los alaveses de los de la llanada en este caso de los de valles que también se han mencionado intentemos entre todos ayudar a que esa situación mejore en lo que no está en manos propiamente dichas

del gobierno vasco y entre tanto tendremos que preocuparnos de aquellos que viven en ese eje de la ene uno en ese eje del ferrocarril en álava central llamémosle como queramos añana

y preocupémonos también del transporte

que en nuestra opinión también es importante por lo tanto insisto tenemos todos una cita importante en breve y creo que será importante que si

herramienta mejor que incidir directamente en los presupuestos generales del estado y para eso creo que algunos de los que enmendaban la moción

agradezco al señor a todos los intervinientes porque todos han reconocido la insuficiencia

han dicho también que apoyan mi proposición no de ley

han reconocido la insuficiencia han reconocido que de momento no se han recuperado

los trenes las frecuencias y que bueno y que las primeras previsiones todavía no está en recuperarlas al cien por ciento no o sea que

el señor arriola yo creo que es bueno para el debate para las actas y para que se vea que efectivamente

lo que me dijo y desde luego es que esa intervención del señor arriola es lo que me llevó a mí a hacer una moción sencilla y clara

respetuosa absolutamente con las competencias porque yo no hacía otra cosa que utilizar el cauce del gobierno vasco para exigir al gobierno

y que lo sepamos y que lo sepamos en este parlamento y que lo sepan los ciudadanos sobre todo que si

grajales debates que afecten a nuestras debates que

a nuestros vecinos y a nuestras vecinas a los contribuyentes en este país y en ese sentido pues tenemos que hacer algo y podemos hacer algo yo creo que además efectivamente en el congreso de los diputados nosotros hemos presentado el grupo popular en el congreso de los diputados ha presentado una iniciativa en relación con instar al gobierno y otros grupos a la recuperación de todos los servicios ferroviarios

que vive euskadi pero que vive el resto de españa y en algunos sitios incluso de una manera más

las el ministerio y el gobierno de españa pues dé cumplida información y se comprometa a esa recuperación

que la pandemia que el covid suponga recortes en la movilidad de los ciudadanos no puede ser afecta íntimamente y esencialmente a nuestra salud

afecte a la movilidad de cuestiones que funcionaban antes cuál es la clave de esta moción bien la exigencia

otra palabra pero yo creo que para recuperar lo que tenemos y ante otra institución

lo otro lo fundamental la clave es recuperar lo que había ese es el asunto y que el covid diecinueve no sea la excusa para el recorte de la movilidad es decir cuál es la clave de esta moción que yo creo que hay que entender por lo que

ayudar al gobierno vasco y que el gobierno vasco cuando tenga que negociar cuando tenga que exigir o que si lo puede hacer o convencer al ministerio de transportes del señor ábalos lo haga con el respaldo del parlamento yo creo que es lo mínimo por eso me decía de contactar

de continuar en las funciones que el gobierno vasco tiene que hacer con los servicios de los ciudadanos bien bien si eso puede ser y podemos hablar de ese desarrollo

de un mandato de este parlamento de un mandato llámelo como quiera o de una sugerencia o de un compromiso de este parlamento en exigir al gobierno central al gobierno de españa que reponga y que recupere esas líneas no yo creo que ese es el elemento fundamental ayudar al gobierno y que el gobierno y que los ciudadanos además en álava vean que el parlamento vasco en álava y en el conjunto del país vasco bien se ha dicho que esto afecta a los tres territorios históricos los ciudadanos vean que el parlamento vasco quiere y se compromete y trabaja por la exigencia de la recuperación de todos esos

de que no se produzca por eso mismo yo creo que no les compromete tanto a ustedes el hecho de apoyar la moción sencilla que yo he presentado porque

y las ciudadanas exigen que se recuperen servicios que había antes es que no estamos hablando de nuevos yo conscientemente no he hablado de mejoras y

de la recuperación de lo que había y ese es el elemento fundamental y tendríamos que dar esa buena noticia a los ciudadanos que el parlamento vasco apoyan a los ciudadanos que hoy se sienten perjudicados y ya para finalizar presidenta

de hábitos claro pero cambiar el tren de cercanías o sea el transporte colectivo

por los coches individuales y por el transporte particular o sea por cientos de coches miles los que puedan ser conforme sumemos los territorios o los espacios territoriales cambiar

o miles de coches individuales pues yo creo que no es cambiar de hábitos es empeorar los hábitos

bai mila esker solo no iba a hacer réplica pero por un par de referencias

creo que o me he explicado o lo ha entendido mal me refería a que no era ninguna marcianada ni la proposición inicial ni la transacción que hemos hecho nosotros tampoco

eso sino que me parece que no es pertinente para el debate nada más no he dicho nada más

me decía el señor grajales que estaba ufano de ser miembro de un gobierno y digo nada más lejos

pero no de eso me decía usted que estaba ufano y no soy miembro de un gobierno

un gobierno en este caso el español y usted hacía referencia a varios grupos ustedes seguramente cuando se presenten los presupuestos generales del estado yo espero verlas

con el ministerio del señor ábalos para que

del noventa y nueve por ciento de los parlamentarios de esta cámara teóricamente estamos y de los parlamentarios estamos a favor de esta medida

la parte proponente que con nosotros tampoco

ha negociado aunque había voluntad por nuestra parte y vamos a respaldar

por esta parte de aquí pero bueno no deja de ser una muestra más que de momento esta legislatura a nivel de diálogo y de acuerdo

eskerrik asko mahaiburu andrea una sí les tengo que reconocer y es que

del interés que tienen en esta cuestión me imagino que tanto el grupo que ha presentado la moción

elkarrekin podemos presenten las consiguientes enmiendas a los presupuestos generales del estado que espero por otra parte con ilusión y que evidentemente

las enmiendas correspondientes para solucionar esta cuestión tengamos el apoyo del partido popular a los presupuestos generales del estado para que de alguna manera el próximo gobierno tenga esos presupuestos y pueda materializar estas cosas que ustedes vienen aquí a demandar

que ha mostrado usted aquí con el gobierno de españa y sinceramente se lo agradezco es una lástima que su voz sea algo parecido

sí le agradecería que llamara a sus compañeros de madrid para que pudiera conminarles a que ese espíritu tan colaborativo

sentido de estado eh bildu hablaba de implementación

nos refiere si no se usan evidentemente es porque no ha habido demanda que permitiera seguir usando esas paradas y que en cualquier caso si se les diera el uso que se les venía dando lógicamente

mermada porque se perdería mucho tiempo para que esa estación no fuera prácticamente utilizada en cualquier caso como viene siendo

la cuestión del tren de cercanías para meterse con el tren de alta velocidad algo que por otra parte es bastante previsible en ustedes y al señor martínez zatón en fin

son bastante cachondos mentales en esta cuestión porque una vez más les tenemos que recordar que ustedes forman parte del gobierno de españa

demagogo que vengan aquí que vengan aquí a exigir a un gobierno del que ustedes forman parte ya me gustaría saber

firmará una enmienda transaccional en la cual se le exige algo a un departamento o un ministerio que ustedes dirigen sean responsables

de su partido que está gobernando en coalición con el partido socialista obrero español

no anden haciendo aquí ejercicios de malabarismo para intentar buscar un perfil que lo único que consiguen

pero todavía no han aprendido la lección de las últimas elecciones autonómicas

lo único que hacen es engordar a estos señores pero no se han dado cuenta todavía que necesitan una pista de aterrizaje para saber exactamente dónde están cuál es su responsabilidad en el gobierno de españa pero todavía no se han enterado señor martínez zatón para colmo esas

califican se traducen en que lo mismo votan a la moción inicial del partido popular

que han firmado con eh bildu si tan de acuerdo estaban haber votado desde un inicio a la moción del partido popular y se hubieran evitado presentar

enmienda en fin creo que una vez más ustedes hacen un ejercicio de lo imposible intentan mostrarse en euskadi como algo que no son y lo que sí le puedo decir es que la ciudadanía nunca va a entender

de venir aquí a exigir a ese mismo gobierno hagan su trabajo hablen con sus compañeros e intenten solucionar los problemas por la vía que hay que solucionar

no les pertenece en cualquier caso según estaba preparando la réplica se me ha ocurrido que no vendría mal y con esto termino señora presidenta escribirle una carta al olentzero

a acuerdos en esta materia en el futuro no lo sé no señor barrio creo que

si usted es el proponente a usted hubiera correspondido por lo menos dirigirse a estos grupos no sé si con aquellos ha estado aquellos ya he visto

han llegado a un acuerdo un acuerdo que me temo no prosperará pero que en cualquier caso tengo que decir también

el señor fernandez de betoño ha mejorado sustancialmente alguna de las propuestas iniciales porque

pues mire en lo que a mí respecta señor martínez zatón yo le puedo reconocer que los alaveses

tener nuestro propio huso horario pero lo que sí creo en todo caso es que los alaveses nos merecemos cierto respeto también

en su punto número dos el parlamento vasco insta al gobierno de españa al gobierno vasco y tal tal tal

no sé si sabe usted que aquí hay una cosa que se llama la autoridad de la movilidad de álava que ya existe y que ya trabaja en estos ámbitos

y en segundo lugar insta usted otra vez a todo el mundo mundial

a que valiéndose de la infraestructura ferroviaria existente reorganice impulse el servicio de cercanías mayores frecuencias mayor regularidad mayor tal tal tal y un cuarto punto

que se analice la idoneidad las posibles ubicaciones de nuevos apeaderos en la ciudad pero oiga

es que todos estos estudios que usted pide que se hagan ya existen es que el grupo de trabajo que usted pide que se cree ya existe yo no sé

en la transaccional ha llevado a un ámbito correcto porque él conoce bastante bien estos estudios en este caso concreto cuando hagan enmiendas por lo menos que tengan cierto contacto con la realidad si no ahí está la respuesta de por qué yo desde luego no me he planteado en ningún segundo

el responsable de haber podido llegar o no a transar esta materia era del señor barrio que en lo que yo conozco ni se ha puesto
en contacto con el señor andueza ni conmigo mismo con ustedes no lo sé muchas gracias eskerrik asko grajales jauna eztabaida amaituta

buenos días gracias señora presidenta buenos días señoras señores parlamentarios en primer lugar decir que la moción que

que el de que nos expliquen por qué votan en esta cámara medidas que luego consideran que es mejor no cumplir o no cumplir en integridad el tres de octubre

que contó con un amplio apoyo y respaldo de esta cámara ustedes deben saber lo que votaron pero yo voy a hacer un resumen para los ciudadanos en esta cámara se votó lo siguiente el parlamento vasco rechaza los actos de reconocimiento con ostentación pública

por una cuestión de sensibilidad y respeto hacia las víctimas y sus familias desde este parlamento se reiteraba la necesidad de garantizar las políticas de reconocimiento

y también en este parlamento se hacía un llamamiento para promover entre la ciudadanía la deslegitimación del uso de la violencia como recurso para la imposición totalitaria de proyectos políticos tanto en el pasado como en el presente como en el futuro

ni futuro el señor erkoreka después de que su partido votara a favor de todas estas medidas se descuelga diciendo que los juzgados centrales de instrucción

a prohibir cautelarmente este tipo de actos y que además prohibirlos sería una vulneración desproporcionada de los derechos fundamentales y nosotros preguntamos y por qué votan a favor por qué engañar de esta forma a los ciudadanos y a las víctimas de eta tomen coherencia y directrices claras

una labor de control de las mismas si no lo hacen ni ustedes visto lo visto vamos a remitirnos a la ley a ver si hacemos que se nos aclare algo a ver si aplicamos la ley que salió de este parlamento la ley cuatro barra dos mil ocho de diecinueve de junio de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo

cuatro relativo a la dignidad de las víctimas los poderes públicos vascos velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos

adoptarán medidas apropiadas para garantizar la seguridad

y la intimidad de las víctimas y sus familiares y en particular para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito

exaltación del terrorismo homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas y actuarán de manera especial contra las pintadas y carteles de tal índole y en su caso

quedando abierta la posibilidad del ejercicio de la acción popular por la administración de la comunidad autónoma del país vasco para la defensa de este derecho

del terrorismo no están solo en los homenajes los vemos cada día en muchos de nuestros pueblos ciudades calles pintadas que permanecen meses

grafitis con las caras de asesinos no sé si lo conocen es el rompeolas

voy a esta playa a veranear unos días y a la que solamente además se puede llegar a este rompeolas en una embarcación es curioso que estas pintadas se mantengan siempre intactas y que no se deterioren ni por efecto del agua del mar ni las inclemencias climatológicas creemos que debe haber un equipo encargado de su mantenimiento

les pongo otro ejemplo algo que todos vemos a diario la clásica insignia de la ultraizquierda

intentan normalizarla y está en nuestras calles y plazas sin que nadie la retire de forma inmediata

instituto de biurrun en navarra en el que estudian jóvenes de doce a dieciocho años menores todos ellos es muy preocupante el odio que se inocula en esta juventud ante la impasividad de nuestras instituciones

que son héroes que dieron la vida por un sueño mentira

no son no son y lo sabemos son asesinos y cómplices de asesinos por qué las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no actúan con inmediatez quién es el responsable de que perduren tanto en el tiempo la equidistancia es un terrible error en estos casos si el parlamento como hemos comentado antes condena y se compromete con las víctimas como así ha dicho

a la policía evitando así estos fenómenos pero si no hacemos nada señorías

de jure ustedes dicen estamos con las víctimas pero de facto parece darles absolutamente igual pues ya que no son coherentes con lo que votan en ocasiones desde vox únicamente queremos que se cumpla la ley

porque desde que votaron en dos mil diecinueve todas esas medidas se han producido en nuestra tierra doscientos actos de exaltación y reconocimiento a esta cuadrilla de asesinos produciendo así un dolor inimaginable a familiares

estos homenajes a miembros de eta deben acabar consideramos que son inhumanos no podemos vitorear a aquellos que pretendían imponer su criterio con el tiro en la nuca

no han renunciado a los principios por los que asesinaron secuestraron y extorsionaron no han pedido perdón por lo cual de arrepentimiento ni hablamos no han colaborado para saber qué ha hecho eta con los desaparecidos

eso supone trescientos setenta y ocho familias destrozadas hijos sin padres ni madres trescientos setenta y ocho vidas rotas

desde vox el partido al cual represento exigimos una defensa de las víctimas del terrorismo que imponga con toda la dureza posible la ley que se votó en este parlamento

destinados a blanquear a la banda terrorista eta y a su historia criminal estamos convencidos de que este parlamento tiene el mismo objetivo y por ello

al gobierno vasco de cualquier duda sobre la voluntad de poner fin a este teatro del terror

el homenaje a asesinos secuestradores y extorsionadores algunos atestados que hemos podido ver no van más allá del número de asistentes horarios y definiciones generalistas de lo sucedido muchos actos celebrados por el entramado político de eta son presentados ante la administración

en la que se va a ocupar una parte de la vía pública nos ocultan constantemente la realidad de lo que se va a celebrar y debemos poner los mecanismos para que esto no vuelva a suceder no podemos permitir que asociaciones que piden una autorización para bailar por ejemplo un aurresku

presentamos esta moción y apelamos a un consenso

queremos contribuir de una manera constructiva a que estas iniciativas desaparezcan de nuestro paisaje

es responsable en estos homenajes y es el responsable de que estos homenajes se sigan celebrando hasta la fecha

el parlamento insta al departamento de seguridad del gobierno vasco a que en el plazo de tres meses desarrolle un protocolo

garantice la correcta investigación de los actos efectuados en público que entrañen descrédito menosprecio o humillación de las víctimas o sus familiares exaltación del terrorismo homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas atendiendo a que se vulnera la ley cuatro barra dos mil ocho de diecinueve de junio de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo

estos protocolos específicos de actuación policial que en otras materias consideradas susceptibles de ser delictivas existen debería consistir en recabar

veraz desde el momento en que se comunica a una administración pública la celebración del acto cuál es el motivo de la celebración a quién van a brindar

en qué va a consistir qué lemas se van a reflejar en las pancartas si es silenciosa o no las consignas que se van a gritar les aseguro que si en ese protocolo que tendría que incidir en la recogida de datos de esa comunicación inicial y en el posterior informe detallado de la ertzaintza aparecieran todos y cada uno de los nombres a los que ha asesinado

esto terminaría de una vez por todas con estos vergonzosos actos que los organizan con el único fin de humillar a las víctimas del terrorismo y describir
un relato falso sobre la banda criminal eskerrik asko

gracias señora presidenta miembros de la mesa miembros del gobierno aquí presentes lehendakari

esta moción tiene su origen en una interpelación que hacía alusión a un homenaje que se llevó a cabo el doce de septiembre en bilbao en la plaza de moyua también conocida como la plaza elíptica

pero lo cierto es que los trámites parlamentarios y los tiempos que tenemos en las cámaras legislativas y de control al gobierno

llevan su tiempo y desde entonces hasta ahora ha habido nuevas ofensas a las víctimas del terrorismo por ejemplo el veintinueve de septiembre

recibieron a la etarra marta igarriz le hicieron un pasillo de honor

cumplió condena de quince años de cárcel por colaboración con el comando amaiur de eta

hace apenas ocho días centenares de personas recibieron en mondragón

otro centenar de personas recibieron a ekhine eizagirre tras ser detenida por la guardia civil

en el que se encontraron distintos tipos de explosivos temporizadores cordón detonante detonadores y otros elementos para la confección de artefactos explosivos

porque a pesar de la pandemia y de estos actos lo cierto es que se siguen sucediendo tenemos que estos son solamente los homenajes propiamente dichos pero si añadimos las llamadas jornadas de lucha las manifestaciones proamnistía y demás actos

de agravio a las víctimas en lo que va de dos mil veinte es difícil llevar la cuenta como digo se trata de un fenómeno que va más señorías en dos mil diecinueve según

fueron del orden de más de un centenar unos ciento diez en dos mil veinte debido a la pandemia

pero bueno ya llevamos unos sesenta y todavía faltan dos meses y medio para acabar el año teniendo en cuenta estos datos parece claro que desde los poderes públicos no estamos haciendo lo suficiente para evitarlo y digo no estamos haciendo lo suficiente porque

y desde las instituciones tenemos la obligación de proteger la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo como se ha dicho antes en la legislatura pasada este parlamento aprobó después de un debate interesante en el diario de sesiones está y yo recomiendo su lectura

en la que se aprobó con un acuerdo muy amplio de esta cámara prácticamente todos los partidos votaron a favor pues que se rechazaba los actos de reconocimiento

que salen de prisión que se instaba a los poderes públicos a que en el marco de sus competencias

que eviten la ofensa la humillación y la revictimización de las víctimas del terrorismo

como recurso para la imposición de proyectos políticos además totalitarios cuál es el resultado un año después comprobamos como sigue habiendo

y otras celebraciones dedicadas a personas condenadas por terrorismo algo estamos haciendo mal

es una costumbre muy española y que los vascos estamos a la cabeza que es el incumplimiento

se quedan ahí y luego no se ejecutan no se llevan a cabo esa es la ley que también se ha mencionado antes que es la ley vasca de reparación de víctimas del terrorismo de dos mil ocho y que además en el programa de gobierno

figura efectivamente la página noventa y uno compromiso número cien que me lo he leído de ciento cincuenta que hay que desarrollar

desarrollando una ley de dos mil ocho doce años hombre ya está bien bien bien tendrán el apoyo para desarrollar esta ley pero hombre doce años

yo creo que era una ley suficientemente importante quienes acabaron con la vida de sus víctimas o les privaron de derechos y libertades

terroristas y actos de acoso esa violencia de baja intensidad que se decía antes no pueden ser recordados y homenajeados como héroes no pueden serlo porque de esa manera se extiende una suerte un tipo de normalización social de estas personas y sobre todo de las conductas que llevaron a cabo

creemos desde la coalición pp ciudadanos que hay que seguir trabajando por lograr un compromiso también social en esta cámara para que se dejen de llevar a cabo este tipo de actos y sobre todo se condenen este tipo de actos y se eviten este tipo de actos

por que la sociedad realmente sea una sociedad libre de este tipo

para las víctimas por eso vamos a votar afirmativamente

en este asunto no puede haber medias tintas o se está con las víctimas o se está

nosotros sabemos muy bien en el lado en el que estamos por eso vamos a llevar a cabo además a impulsar otra suerte de iniciativas a lo largo de la legislatura

no basta con acabar con los homenajes a personas condenadas por terrorismo no basta

para alcanzar eso que se llama la normalización de la sociedad o algunos llaman el mínimo ético en euskadi tiene que haber homenajes pero homenajes del otro lado homenajes a las víctimas no a los verdugos

sus miembros son muchos de ellos parte del gobierno anterior que se han llevado a cabo iniciativas

además yo creo que de corazón pero se puede hacer mucho más todas las víctimas deben tener un espacio de recuerdo y de conmemoración en los propios lugares de perpetración de los crímenes lugares que tienen que ser además protegidos porque

estos lugares pues tienen que ser sancionados tienen que ser castigados tiene que haber un acto de deslegitimación de este tipo de conductas porque si no hay un acto de deslegitimación

se le quita la importancia y como digo esto contribuye a que

a las víctimas el trato que realmente merecen hace justo un mes fue saboteada

no fue la primera vez ni va a ser la última ya lo sabemos no es la única víctima a la que le hacen algo así

es que además hay que seguir mostrando el odio cuando la memoria de las víctimas es mancillada

a los que se han quedado aquí a sus familiares a sus amigos es necesario por tanto y vuelvo a insistir

social y pública de todo tipo de actuación que contravenga la memoria de las víctimas por eso

como este que ha originado esta moción no pueden quedar impunes y hay que poner todos los recursos a disposición de las autoridades públicas para identificar a los culpables localizarlos y sancionarlos la sociedad vasca y ya voy terminando tiene mucho que avanzar tenemos mucho que avanzar todavía

las víctimas del terrorismo son una referencia ética y moral para euskadi y para toda españa mientras siga habiendo un solo acto de homenaje a un verdugo o un ataque a una víctima no habrá verdadera convivencia

nosotros estaremos aquí para denunciarlo y para apoyar todas las iniciativas en este sentido por todo ello nosotros vamos a votar a favor

voy a ser muy breve en esta segunda intervención creo que lo que hemos propuesto técnicamente es sencillo llevarlo a cabo y además estoy casi segura de que la mayoría de los miembros de esta cámara aunque no se hayan posicionado exceptuando a los que se sitúan a mi izquierda en su interior

sin importar en este caso las diferencias ideológicas y políticas que puedan existir entre nosotros solo pretendemos afianzar el relato de este parlamento

y que la actividad parlamentaria pueda ser útil para que se deje de humillar a las víctimas del terrorismo un terrorismo criminal que cometió

ochocientos sesenta y cuatro asesinatos y hay más de siete mil víctimas permítanme además también añadir un punto que es de

doscientos ocho han sido miembros de la guardia civil ciento cuarenta y nueve policías nacionales ochenta y seis militares treinta y dos políticos veinticuatro policías municipales

nuestro cuerpo de policía diez profesionales de la administración de justicia y un mosso desquadra qué les parece este relato terrible verdad

que han contribuido activamente a la desaparición de este grupo terrorista y que ha sido uno de los grupos que más sangre ha puesto ante esta banda criminal no lo olvidemos ciudadanos honrados trabajadores que les destinan a esta tierra para defender nuestra libertad y la libertad de todos los vascos que estamos amenazados por eta

y por supuesto siguen haciendo una gran labor en nuestra sociedad contribuyendo a la seguridad de todos los ciudadanos

solo me cabe decir menos alde hemendik y más

que recoge las líneas generales de programación de la e i te be

y no actualizado a dos mil veinte publicado en la web oficial del ente

basado en los valores que su apartado dos punto dos recuerda no se incitará al odio la discriminación por razones de género raza o cualquier otra circunstancia personal o social

referente al derecho de participación y que alude al respeto como modelo de garantía para terceros no lesivos a otras personas grupos o instituciones públicas o privadas

que se refleja en que la e i te be debe diferenciar claramente la información de la opinión

objetivo de los hechos sin opinión o juicios de valor del o la periodista se ignora descaradamente los principios básicos de la información veracidad

mostrando únicamente un sesgo interesado manipulado y con claras intenciones ideológicas contrarias a la propia constitución y a la democracia pero es que además

que en su contrato programa de calidad dicen garantizar la información de calidad con contenidos que sean fiel reflejo de la realidad debidamente contrastados les digo son las familias de doscientos ocho personas que han sido asesinadas por ser funcionarios del estado miembros de un cuerpo ejemplar que ha realizado labores extraordinarias

y la televisión pública vasca se dedica a blanquear el discurso de los terroristas para señalar este cuerpo como justificación de la violencia criminal de eta

sería desterrar de la cadena pública un reportaje de estas características que está muy cerca si no lo hace de la justificación moral del terrorismo muchas gracias

antes hacía alusión en mi primera intervención y ahora seré también muy breve a una reflexión que además creo que es una reflexión colectiva no solamente una reflexión

que hemos intervenido el resto de grupos que están en la cámara es qué se está haciendo mal qué estamos haciendo mal para que todavía hoy en día se sucedan este tipo de homenajes este tipo de actos yo

mismo y es dejar de mirar realmente para otro lado en todos los ámbitos yo por eso creo que el punto fundamental de lo que tenemos que hacer para acabar con este tipo de actos y deslegitimar realmente este tipo de actuaciones

hay que combatir los actos de enaltecimiento del terrorismo eso es evidente corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

un reconocimiento social e institucional de las víctimas del terrorismo de eta y en tercer lugar

en las instituciones públicas las que ejercen el poder público en colegios en institutos y en los medios de comunicación